eta legebiltzar honetan adostasunik eta handiena lortuko duen lege bat martxan jartzea el objetivo por tanto es el de configurar un texto final con el mayor consenso posible basado en un texto de referencia remitido por el gobierno

ley de sostenibilidad energética es que se va a aplicar en la administración de la comunidad autónoma de euskadi así como en los tres territorios históricos y en los municipios

única y exclusivamente a la gestión de edificios y a la movilidad en los vehículos de las administraciones

y entre ellos cabe citar la de la reducción del consumo de energía en un veinticinco por ciento para el año dos mil veinticinco la de elaborar auditorías y planes de eficiencia como de movilidad encaminadas a reducir el consumo que en el dos mil veinticinco al menos el veinticinco por ciento de los edificios de la administración

o que el cien por ciento de la flota renovada deberá usar combustibles alternativos a partir del año dos mil veinte decía que este proyecto de ley se enmarca dentro de la estrategia tres e veinte treinta que es la que guías las actuaciones

y que establece entre otros objetivos la de intensificar actuaciones que nos lleven a la eficiencia energética y a que entre todos los sectores reduzcamos el consumo en equivalente en en

queremos ser una administración pública responsable ejemplar y referente en este tipo de actuaciones y por ello debemos impulsar actuaciones que nos lleven

conseguir todos estos objetivos que nos hemos marcado el proyecto de ley presentado se estructura en tres capítulos con tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales además de los objetivos citados cabe señalar que para conseguir una reducción del consumo del veinticinco por ciento para el año dos mil veinticinco se establecen unos objetivos secundarios que pueden ser citados a continuación entre los que cabe señalar el de impulsar la

promocionar e implantar instalaciones de energías renovables

progresivamente el uso del petróleo promocionar y fomentar el transporte con combustibles alternativos

reducir la factura energética de la administración o promocionar y fomentar la investigación y desarrollo en técnicas y tecnologías que ayuden al ahorro de la energía en definitiva se trata de conseguir esos cuatro objetivos principales que nos hemos y que a través de las actuaciones en edificios públicos y en movilidad consigamos llegar a esos objetivos planteados

se recoge que cada administración contará con una comisión de sostenibilidad energética y que para los municipios de más de veinticinco mil habitantes deberá crearse en el plazo de un año desde la aprobación de la ley y en los municipios de entre cinco mil y veinticinco mil a partir de dos años desde la aprobación de la ley

y deberá supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley informar periódicamente sobre el estado de su plan de acción y realizar un informe que recoja todas estas actuaciones las acciones principales que se recogen en este proyecto de ley es la de evidentemente realizar ese inventario un inventario de y de parquee móvil e instalaciones de alumbrado público midiendo su consumo y gasto energético en cada uno de los edificios por separado y en cada uno de los elementos de movilidad y de alumbrado público es decir diferenciando cada una de las actuaciones además se procederá a realizar un control de los consumos que en el plazo de un año

deberán disponer de contadores de energía que midan consumo asimismo se realizarán auditorias energéticas en el plazo de tres años y en los edificios públicos que tengan una potencia instalada superior

se realizará un diagnóstico del consumo y se establecerán medidas para reducir el consumo además se establecerán planes de acción energética

de las fuentes de consumo incluidas como hemos dicho edificios alumbrado público y movilidad y se

puestas en marcha en la ley el uso de energía procedente de energías renovables deberá hacerse constar que cada administración en dos mil veinticinco tendrá al menos un veinticinco por ciento de sus edificios decíamos con instalaciones de aprovechamiento de energías renovables y además

renovable de la misma y se podrá exigir que el diez por ciento de la energía adquirida sea energía verde siempre y cuando ello fuera económicamente razonable además se procederá a la renovación de equipamiento de instalaciones de servicios

en edificios públicos deberán tener un alto rendimiento energético buscando aquellas instalaciones aquellos equipos que pertenezcan a la clase de eficiencia energética más elevada asimismo se establecerán sistemas de gestión centralizada en el caso de que

produciendo y respecto a los vehículos se considerará su ciclo de vida

móviles de la administración en cuanto a los edificios las medidas que se deben cumplir son las que los edificios de la administración

de un certificado de eficiencia energética en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley que el veinticinco por ciento de los edificios existentes en cada administración cuyo nivel de calificación energética sea inferior al b

aunque se establecerán excepciones en aquellos edificios de valor arquitectónico o histórico especial lugares de culto o instalaciones provisionales

la ley de sostenibilidad energética supuestamente está enlazada y tiene una coherencia con la estrategia energética dos mil treinta

se puede leer algo que me parece fundamental y cito en el diagnóstico de situación la estrategia de desarrollo sostenible

amenazas al sistema de bienestar dos se encuentran relacionadas con la energía el agotamiento de los recursos entre ellos los energéticos fósiles

ligado también al modelo energético vigente repito de las tres principales amenazas a nuestro bienestar dos están directamente relacionadas con la energía

ehuneko laurogeia suposatzen dute eta hemen gehiago según los últimos datos de ihobe el sector energético emite el treinta y cinco por ciento de las emisiones

el veintiuno por ciento todos relacionados con la quema de combustibles fósiles en total un ochenta y seis por ciento de las emisiones

energética del noventa y tres por ciento de las más altas de europa

estos son los valores petróleo gas natural

renovables y parte de las importaciones eléctricas

el año dos mil dieciséis últimos datos publicados

xahutu gabe es decir la sostenibilidad que se supone que es de lo que va la ley se basa

sin comprometer las necesidades de futuras generaciones dicho esto que es bastante obvio

para darse cuenta de que nuestro sistema de vida no es sostenible en la medida en la que desde un punto de vista energético

está basado al ochenta por ciento en materias primas energéticas que no son renovables

es complicado hablar de sostenibilidad y no es ni renovable ni reciclable es decir yo uso metal para hacer un motor

pero yo la gasolina que quemo en ese motor ya no la voy a poder utilizar y entender esto es fundamental y no puedo entretenerme mucho pero creo que establecer bien

pues es importante a la hora de desarrollar cualquier cosa y en este caso una ley así que no se puede hablar de sostenibilidad energética con un ochenta por ciento de consumo no renovable y calentando el planeta en todo caso podríamos hablar de una transición hacia un modelo sostenible

y no va acorde con lo que yo diría que hoy día es un consenso mundial y si no mírese el energiewende de alemania la transition énergétique de francia

lo podemos decir en cualquier idioma pero hay un consenso beraz hau dena lotuz guretzako premiazko kontua da

hau alderatzeko y a pesar de no haber tenido un debate en profundidad ahora llegan un montón de enmiendas

hacen como que regulan el sector privado pero lo que hacen es

en la superficie y lo mejor es echar un vistazo cómo han sido redactadas las enmiendas para que se me entienda

enmienda treinta y siete de adición artículo treinta y nueve obligaciones del sector residencial en edificios existentes apartado a deberán disponer de sistemas

b auditoría según se regule por normativa cien en la forma y los plazos que reglamentariamente se establezcan

e para fomentar la sustitución se establecerán las medidas regulatorias pertinentes f las comunidades de viviendas existentes reglamentariamente se regularán los criterios

los garajes comunitarios se regularán los criterios y las condiciones claro

y después todo se queda en manos del gobierno enmienda cuarenta y dos requisitos a flotas de transporte privado con la periodicidad que se determine

que cumplan los criterios que se establezcan tendrán flotas sistemas alternativos en los términos que reglamentariamente se desarrollen no sabemos ni cuándo no sabemos con qué criterios no sabemos en qué términos

todo lo que viene a regular la parte del sector privado todo es así todo es así o sea aquí lo que se viene a pedir es un cheque en blanco porque claro siempre se quedan cosas para definir pero todo por definir todo hemos pasado de veintiocho artículos a sesenta y ocho y estos cuarenta artículos no ha habido ningún tipo de análisis

ningún tipo de debate no está analizado ni lo que supone ni lo que cuesta ni nada se ha improvisado

y aquí es donde me sorprende y apelo también al resto de la oposición

porque al final lo que se está a punto de hacer

gobierna hasta el tato o sea es que eta horregatik gure ustez

ez du aipamenik ere egiten claro este problema se detectó desde un inicio no solo nosotros eudel los subrayó varias veces

tenemos encima de la mesa una enmienda aparte de la nuestra que hemos metido un capítulo entero una enmienda que yo creo que es pues diría que completamente insuficiente porque en una enmienda de podemos que dice que en el ejercicio presupuestario siguiente

la administración articulará los instrumentos financieros para que las actuaciones previstas se puedan hacer efectivas

de cuáles de qué cantidades de quién lo va a gestionar no sabemos qué aportaciones va a tener de cada institución

ya veremos lo que se hará hirugarren

en consumo energético final teniendo en cuenta que la mitad de la

renovable pues este veintiuno por ciento en real se quedaría no sé el objetivo podría ser doce trece catorce como mucho como mucho pero es igual llegamos al veintiuno

pero es que con esta ley estamos hablando de conseguir

un trece coma nueve por ciento y décimos que somos ambiciosos no es ambiciosa ni la ley no es ambiciosa la estrategia energética de la que cuelga la ley así que

todos estos objetivos son ciertamente ambiciosos pero solo si se es ambicioso es posible que se puedan lograr

que yo no digo que sea fácil ni llegar a esos mínimos que nos hemos marcado

es complicado pero no nos hagamos trampas porque nos hacemos trampas décimos que somos ambiciosos cuando no lo somos ambiciosa es dinamarca

y calor el dos mil treinta y cinco ambicioso está siendo baleares que están tramitando ahora el proyecto de ley de cambio climático y transición energética lo están enfocando un poco mejor objetivo dos mil cincuenta cien por ciento renovable

con gasoil o gasolina en las islas a partir del año dos mil treinta y cinco así que el que tenga planes

treinta y cinco por ciento de renovables para el año dos mil treinta treinta y cinco por ciento renovables para el año dos mil treinta y no parten de una situación buena nafarroa

del cuarenta por ciento para el dos mil treinta con respecto a los niveles de mil novecientos noventa

de un rango de treinta y cinco por ciento cuarenta por ciento depende del plan que miremos porque no dice lo mismo la estrategia energética

clima dos mil cincuenta la estrategia de lucha contra el cambio climático que ese es otro de los problemas que no no conseguimos juntarlo y luego resulta que tenemos objetivos diferentes

en dos mil treinta habla de aumentar hasta el treinta y dos por ciento el peso de las energías renovables

así que ambiciosos no diría bueno laugarrena

dos semanas el gobierno balear ha presentado el ante proyecto de ley del cambio climático y transición energética

medios y colaboración de todos y todas el consejero que le acompaña explica que la propuesta de ley

con más de dos mil personas haciendo aportaciones y se ha hecho con multitud de reuniones con distintos sectores económicos y sociales para garantizar le efectividad de las medidas a tomar en francia se aprobó la ley de transición energética en el año dos mil quince

con un plan de transición energética en dos años hay un proceso para conseguir la participación de todos los agentes del sector se tiene en cuenta

de la autoridad ambiental del comité de expertos para la transición energética después se organizan talleres temáticos abiertos a todas las partes interesadas partidos políticos sindicatos

asociaciones que representan a comunidades locales bajo la supervisión de un comité de seguimiento

presentaciones reuniones y después de todo esto la consulta pública

algo que creo que es importante decía es la primera vez que una gran potencia industrial involucra a la sociedad civil en la definición de su estrategia energética cuento con ustedes para continuar expandiendo este proyecto y hacerlo suyo en su día

para el éxito de la transición energética el compromiso de todos es esencial para el éxito de la transición energética y aquí cómo se ha ido haciendo bueno pues se aprobó en diciembre del dos mil dieciséis

sin dar cuenta del plan anterior del dos mil once dos mil veinte

se plantea otro plan en julio del dos mil dieciséis el que está en vigor cambiando además un montón de objetivos en siete meses y ahora la ley se ha escrito

y los partidos que apoyan al gobierno además sabiendo

no pidieron ni una sola comparecencia yo creo que el partido popular tampoco

y los contrastes de estos artículos y la participación en la ampliación quién ha tomado parte en esto amaitzen joateko nik aurkeztu den

realmente me parece asombroso habla de la energía un poco así como muy en general y luego menciona problemas

sobre los problemas dice esto ahora bien el consumo energético presenta distintos problemas por una parte se trata de utilizar la energía lo más posible de la manera lo más eficiente posible sin explicar nada de por qué se trata cómo se trata nada lo que constituye un evidente reto en las sociedades actuales en términos físicos y económicos por otra y para mí esto es lo más gordo está el problema de las emisiones o sea está el problema de las emisiones tenemos un problemita por ahí si estamos diciendo que el tema del cambio climático

de los tres retos más importantes para mantener nuestro bienestar cómo se puede hablar del cambio climático diciendo está el problema de las emisiones

que reduzcan significativamente dichas emisiones por medio entre otros de la sostenibilidad energética

la sostenibilidad energética es que es que no entiendo cómo se entiende alguien tiene que bajar y explicármelo

porque la sostenibilidad energética será aquel estadio

en la que entendamos que esto es sostenible en el tiempo durante generaciones pero a través de la sostenibilidad energética es decir es que no entiendo ni de lo que se habla entonces

entiendo que esto está el problema de las emisiones es algo que a ellos les suena un poco lejano de todos modos y para ir terminando no me da tiempo

esta ley tiene peligros y el mayor peligro que tiene es que se quede mirando un poco a lo pequeño

el elefante en la sala o mejor dicho los elefantes en la sala

uno y no me da tiempo es primero

la dependencia al gas y el lio que tenemos con la generación eléctrica

generación renovable propia para un ochenta y cinco por ciento y claro cuando hablamos de electrificación tenemos un problema porque si vamos a hacer un pan con unas tortas o sea primero tendrá que venir

y después podemos hablar de algo que se empiece a parecer a un camino a la sostenibilidad sobre el petróleo tenemos otro problema y es una vez más el consumo del petróleo

desvincular eso los datos de los dos últimos años en emisiones también están subiendo y la dependencia al petróleo que uno

han intentado o lo han puesto en el objetivo

enseñarla haber cuando conseguimos que nos dejen

desde el año ochenta y dos con el eve después de las crisis de los años setenta

reducir la dependencia del petróleo ahora somos más o menos dependientes del petróleo claro si miramos el consumo del petróleo en términos de consumo final resulta que en los años ochenta estamos por aquí

viene la crisis y no otra cosa nos mete un tortazo en el consumo del petróleo pero ahora resulta que hemos vuelto en el año dos mil siete al pico

en términos absolutos del petróleo con lo cual no estamos consiguiendo nada y seguimos presentando los datos de aumento de consumo de gas

y que además eso está bien porque se ponen en marcha los ciclos combinados cuando resulta que claro esto viene porque

obligó el año pasado a bajar la producción hidroeléctrica en un cuarenta y tantos por ciento entonces tenemos un lio aquí con que crecemos

tiramos de consumo entonces tiramos de consumo energético y resulta que eso nos está dando problemas en las emisiones como se está viendo y nos está dando cada vez más problemas en la dependencia y ese es el elefante en la sala

es el interés público y el interés privado luego igual después explico un poquito más esto

nosotros pedimos queremos y a través de las enmiendas lo hemos hecho queremos que el eve sea una institución fuerte

que la energía es un asunto público en la medida en que es un reto colectivo en esta sociedad cuando lo entendemos así en seguridad

pero ponemos miles de personas a trabajar en esto del erario público y resulta que la energía que es un tema de los fundamentales tenemos al eve con sesenta y seis personas sesenta y seis frente a cuántos miles hay en osakidetza cuántos miles hay en la ertzaintza cuántos miles hay en educación claro si la energía

público pero de interés económico privado de ganancia privada tenemos un problema y esta ley como todas las leyes que hay que hacen energía tendrán que ir encaminadas

sí gracias presidenta y buenos días a todos en primer lugar agradecer al señor otero el tono porque efectivamente el que presenta una enmienda a la totalidad con el

para agradecer y antes de pasar a la intervención que yo había preparado que era un poco más genérica explicando el por qué estábamos en contra el grupo socialista de su enmienda a la totalidad sí que le quería decir que

la importancia o no que un departamento da a un proyecto de ley o un decreto o a cualquier tema no se mide por el número de trabajadores que tiene una dirección un departamento

muy general creo que pensar que por que el eve tiene un número determinado de trabajadores el gobierno vasco en este caso el departamento que dirige la señora tapia no da importancia a ese proyecto

nos ha hablado de otras comunidades autónomas nos ha puesto en concreto la comunidad autónoma de baleares que la preside una socialista como francina armengol efectivamente yo

que la situación y el que tiene el gobierno vasco la situación ni presupuestaria ni de tejido industrial

por lo tanto también me parece hacer comparaciones que efectivamente todo no se puede comparar o al menos no de una forma tan general puedo compartir con usted y comparto además que efectivamente es un debate importante y es un debate urgente hemos dicho muchas veces en esta tribuna que el tema de la energía es una asignatura pendiente

pero que efectivamente es necesario poner sobre la mesa y sobre en este caso el parlamento vasco proyectos de ley para que todos los partidos políticos podamos debatir y podamos aportar y también comparto con usted que efectivamente el trabajo de la ponencia es un trabajo que va a ser importante

ha dicho y esperemos que a partir de ese debate seamos capaces de llegar al máximo acuerdo posible porque sí comparto con usted que esta ley tiene que tener

otras instituciones como son los ayuntamientos y todos los ámbitos de la sociedad a los que les va a afectar la aprobación de esta ley como es el tema como son

y por eso digo que un mayor apoyo de esta cámara creo que redundará en el beneficio de lo que aquí apoyemos por tanto decirle que este tema ya se abordó también a lo largo de la noveno legislatura cuando gobernaba

a poder tramitarse porque hay una convocatoria electoral y nada más comenzar esta legislatura el gobierno vasco que lidera el señor urkullu plantea como una de sus prioridades

ha cumplido con el calendario legislativo y hoy empezamos a trabajar después de aquellas comparecencias que efectivamente pidió podemos y eh bildu y que los partidos del gobierno no pidieron porque entendían que tienen claro el proyecto energético que quieren

y conocíamos tampoco hay que ser muy avispado en esto todas las comparecencias que iban a pedir ustedes

porque ya somos viejos conocidos en lo que tiene que ver con la petición de comparecencias en este y en otros temas sabíamos que nos iban a desbordar con ellas fueron más generosos de lo que creíamos

y seguramente muchas de las cosas que se dijeron se tendrán en cuenta al menos para enriquecer el debate de los diferentes partidos políticos a principios del año dos mil doce se disponía ya del borrador como le digo a lo largo de la pasada legislatura se aborda el asunto de la certificación energética de los edificios y la sostenibilidad de las administraciones vascas a través de un decreto que se aprueba en septiembre del quince

y del proyecto de ley aprobado el pasado mes de julio del dieciséis quiere decir que había temas pendientes y que el gobierno lo reconocía y por eso sí se fueron dando pasos

los mandatos europeos que todos conocemos y que entendemos deben cumplirse y la normativa que ya existe en el ámbito estatal porque no olvidemos que el tema de la energía el gobierno de españa tiene mucha competencia tiene mucho que decir y también marca límites

y en el caso de euskadi además los datos de dependencia energética nos obligan a trabajar en medidas que garanticen esa eficacia y esa eficiencia cada día se consume más

y la apuesta de los gobiernos por terminar con los combustibles fósiles y por apostar por las renovables es una realidad a partir de esa ponencia hablaremos además de todo lo que supone esto porque todos reconocemos que hay un mayor consumo que hay una mayor demanda pero no terminamos de ponernos de acuerdo en cómo afrontar

la ley persigue el impulso y promoción del ahorro y eficiencia en el uso de la energía sin olvidar el componente ambiental mediante la implantación de instalaciones de energías

era más concreto se circunscribía a las administraciones públicas vascas pero el gobierno entendió que había que ampliarlo para así ser capaz de dar respuesta a ámbitos como el sector industrial residencial transporte así como a las actividades económicas

que el resultado de este proyecto de ley sí es más ambicioso señor otero más completo y también más complejo puesto que dificulta

porque el gobierno se podía haber quedado en una afección solo a la administración pública vasca y hubiera sido mucho más fácil

que qué poca ambición tenía ese gobierno que solo quería una ley para aplicar a la administración

usted aquí entendemos que muestra una preocupación por parte de eh bildu

trabajaremos todos desde luego mi grupo lo hará para poder lograr el mayor acuerdo posible

debiera ir secundado por el mayor número de votos posibles es una ley que afecta a los ciudadanos

energético de euskadi que ha llegado la hora de que comencemos a poner

después de trabajar el proyecto de ley entendemos que habrá importantes avances podríamos hablar por ejemplo que en el tema de la empresa se podrá hablar de auditorías

de obligación y actuación energética en el tema de los particulares un acceso mayor a la información un análisis del comportamiento energético de una vivienda y en lo que tiene que ver con los vehículos

más paga usted sabe perfectamente lo complicado que es abarcar el tema del transporte en una comunidad autónoma con un tejido industrial que obliga a que el transporte sea necesario

por tanto y por concluir el grupo parlamentario socialista votará en contra de su enmienda a la totalidad por varios motivos uno

y echarlo para atrás sería tener que empezar de cero y perder

dos porque el trabajo presentado a través de enmiendas por parte de los grupos que sustentan al gobierno completa y aborda asuntos que en el texto inicial no estaban que creemos que enriquece

el contenido del proyecto de ley y que aborda temas que obviamente los grupos de la oposición hubieran traído a través de enmiendas tres

como un tema que no puede tener una demora mayor y cuatro aunque podría ser muchos más porque la ponencia es una oportunidad para llegar a acuerdos y lograr una ley consensuada ambiciosa y que sea capaz de dar respuesta a los retos energéticos de euskadi me quedo con el tono señor otero me quedo con la intencionalidad de eh bildu de

y confiada en que a la hora de votar el proyecto de ley final pues sea aprobado por un

pero por un importante número de parlamentarios de esta cámara nada más muchas gracias eskerrik asko rojo

eta horrexegatik ez dugu eh bilduk aurkeztu duen osoko emendakina babestuko por qué no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad

en primer lugar porque euskadi necesita ya una ley y eso lo ha reconocido el señor otero

y precisamente porque necesita que esta ley sea buena se precisa una actitud constructiva para

por eso nuestro grupo ha presentado setenta y siete enmiendas parciales y por eso nuestro grupo no va a bloquear la tramitación sino que la va a facilitar

necesitamos una actitud constructiva para promocionar el ahorro energético porque esta es una cuestión clave para el futuro de la sociedad vasca es una cuestión clave para nuestras empresas porque necesitamos un tejido industrial más moderno y más sostenible que sea

y porque necesitamos que nuestro tejido empresarial reduzca sus costes energéticos que entre el dos mil cinco y dos mil quince se han incrementado un sesenta y tres por ciento

ahorro y eficiencia es clave el ahorro energético para la ciudadanía

de las empresas ha subido un sesenta y tres por ciento el de las familias ha subido un ciento diez por ciento entre dos mil cinco y dos mil quince y necesitamos evitar las situaciones de pobreza energética que ahora mismo

o paliarlas y mejorar las economías familiares a través del ahorro y la eficiencia si los sueldos no se incrementan al menos que no se sigan incrementando

porque nuestras administraciones locales necesitan equilibrar sus cuentas públicas

el alumbrado público la calefacción de los edificios municipales

pero además necesitamos a la administración local necesitamos que

se incremente y se acerque la concienciación ciudadana sobre la necesaria transición energética se ha referido el señor otero a las amenazas

al bienestar de nuestra sociedad amenazas reales que existen primera se están agotando las fuentes de energía fósil barata y segunda tenemos la espada de damocles del cambio climático la estrategia vasca de cambio climático

cómo hacer eso bien la propia agencia internacional de la energía dice que para reducir nuestras emisiones hay dos vías dos patas exclusivamente una

promover las energías renovables y esta es una de las dos patas el ahorro y la eficiencia energética por lo tanto

para promover este ahorro y eficiencia energética las enmiendas que ha presentado nuestro grupo lo que persiguen es fundamentalmente a que esta ley sea más amplia y efectiva y que abarque no solamente a la administración pública sino a sectores económicos como la industria el transporte la vivienda o los servicios b que sea una ley

se necesita tener financiación para las administraciones municipales que sea una ley vinculante y para eso se necesita un régimen sancionador que sea una ley

y objetivos de mejora concretos y por último se necesita una ley que involucre a la ciudadanía

en este tránsito hacia un modelo energético beraz azpimarratu behar dugu gaur

energia trantsizioa hasi behar dugula eta hori da gure helburu nagusia nuestro objetivo como estaba diciendo es que tengamos una ley que inicie la transición

y para eso se necesita un acuerdo lo más amplio posible para tener la mejor ley la más efectiva la más ambiciosa y la más vinculante nuestro grupo en ningún caso

porque lo que pretendemos es que en efecto dentro de unos meses tengamos al menos el primer paso de la transición energética que necesita este país gracias

y debemos reducir como indica usted a corto plazo la dependencia de las fuentes de energía fósiles y yo añadiría debemos reducir la dependencia así sin más

estamos de acuerdo en que nuestro modelo energético atraviesa un momento determinante que deberá asentar las bases de un crecimiento sostenible en una economía descarbonizada y en esta coyuntura las administraciones públicas deben pasar a la acción y dar un paso decidido hacia la transición del modelo energético este cambio

es una oportunidad que no debemos desaprovechar y no debemos ni podemos centrarnos única y exclusivamente en la producción como decía el señor becerra ahorro y eficiencia son la otra pata de este camino esta transición requerirá actuaciones que permitan cambiar patrones y modos de consumo

este cambio puede y debe producirse mientras se mantiene razonable de energía para los usuarios y se garantiza en todo momento

aprovechan ustedes el trámite de una ley en principio destinada únicamente al ahorro y a la eficiencia de las administraciones públicas

y cambio climático eta gu horrekin ez gaude ados pensamos que usted confunde o pretende confundir el todo con una parte

desde la creación del eve del ente vasco de la energía nuestro modelo

han mejorado las políticas y la concienciación social en una sociedad que consume energía de manera intensiva pero también por qué no decirlo ha mejorado pese a que usted diga lo contrario infinitamente nuestro mix en el que el carbón y el petróleo

a los datos de hace treinta y cinco años por no hablar del compromiso en la lucha contra el cambio climático de todos nuestros niveles administrativos y de todas nuestras políticas públicas

en un momento en el que como usted decía europa se está planteando cambiar los parámetros establecidos por qué nosotros que además no tenemos todas las competencias

sinceramente señor otero creemos que nuestra estrategia energética

dos mil treinta cubre con esa función de paraguas de elemento central y nos permite ser mucho más agiles a la hora de marcar criterios de intervenir de analizar de sacar conclusiones de corregir aquello que no se esté haciendo lo suficientemente bien porque la transición energética no va a ser un proceso lineal ninguno de nosotros

saber claramente por dónde van a venir qué nuevas tecnologías se van a desarrollar y por eso pensamos que las políticas que se desarrollen necesitan mantener la mayor cantidad de opciones abiertas y gracias a esta estrategia ya tenemos una visión integrada y acorde a los planteamientos actuales de europa

y que a lo más podría ser un sub apartado de la ley que dicen ustedes que se necesita y así es la eficiencia energética es un sub apartado de nuestra estrategia energética junto a otras siete áreas de actuación que la componen por qué como digo una única ley cuando ya tenemos una visión global

vamos avanzando en el ámbito que nos compete también el que nos incumbe sin renunciar a seguir impulsando normas adicionales en el futuro

cuando todo el mundo sabe que la energía que menos contamina es la que no se utiliza dicen ustedes que el texto presentado no responde a los principales retos energéticos del país

bien importante sin duda uno de los más importantes piden que se devuelva al gobierno y piden un montón de informes y nos ponen a francia como ejemplo

las energías renovables en alemania y siempre cuando habla de generación y se deja el carbón de lado

ha pasado usted no de puntillas sino que ni ha pasado cuando habla de generación y no ha hablado de la dependencia que tienen en francia por ejemplo

de la energía nuclear y como siempre por qué en este país las energías renovables han tenido el desarrollo que ha tenido y qué ha tenido que ver cada uno en ese desarrollo o en ese no desarrollo

ergo si les hiciesemos caso tendríamos que esperar tres años como mínimo para traer otro texto entonces yo no sé si esto urge no urge

este proyecto de ley se ha hecho a humo de pajas sin análisis sin reflexión sin debate

el cuerpo de esta ley plantea medidas de fomento de la eficiencia que tiene efectos positivos netos en los ámbitos que plantea y las medidas se derivan del trabajo técnico y de la experiencia reconocida ampliamente por todo el mundo menos por lo visto ustedes del ente vasco de la energía

el tato no ese que yo sepa no ha participado en la redacción de la ley

porque lo difícil es ponerse a las manos es ponerse manos a la obra y aportar

a la demagogia y por eso esta ley contará no solo para las administraciones públicas sino para otros sectores privados fundamentales

la vivienda los servicios o transporte por lo tanto otro argumento que se cae de su enmienda

de que la ley adolece diferencias carencias estructurales de las que destacan cuatro a las que intentaré contestarles brevemente en primer lugar hablan ustedes de ausencia de participación cuando esta ley como en su día la estrategia

han tenido sus correspondientes procesos de participación y en el caso de esta última ni siquiera era obligatorio pero digo yo que el que los interpelados no quieran participar no será culpa de la señora tapia

no quieren participar tengo la sensación en cualquier caso de que últimamente se apela a la participación más que como un instrumento al servicio de la sociedad como un instrumento para mejorar las leyes o incluso la convivencia tengo la sensación que últimamente la utilizamos mucho como un mantra para intentar proseguir por otros medios

y respecto a dar la voz en el desarrollo de la ley a personas o colectivos interesados tenían ustedes también la herramienta a la enmienda parcial y quien busca

porque quien busca el beneficio social y el avance de la sociedad trabaja el acuerdo y huye de los maximalismos y habrá participación ciudadana

con lo cual otro argumento que cae en segundo lugar hablan de falta de ambición en los objetivos aquí sí que no coincidimos ni en el fondo ni en la forma dice que el porcentaje de energía de consumo en las administraciones es mínimo y no es así

una parte sustancial de la energía que contrata el gobierno vasco

y cada vez son más las administraciones que optan por estas energías

pero hace caso omiso a que europa personaliza sus objetivos para los diferentes estados y que como nosotros no tenemos la suerte

es sustancialmente diferente en muchos ámbitos a la del estado en el que a día de hoy vivimos realquilados hemos hecho una adaptación de los objetivos en la tres e y planteamos adecuarnos a ella con lo cual otro argumento en mi opinión que se cae en tercer lugar o mejor dicho su ausencia este asunto se ha planteado también a través de enmiendas parciales y coincide plenamente con nuestras propias inquietudes por ello buscaremos las maneras para facilitar el acceso a la financiación a aquellos municipios que lo necesiten

que conlleva mejoras del gasto corriente casi de manera inmediata

lo que contribuirá muy positivamente en el día a día no solo de los ayuntamientos sino de los municipios y finalmente se quejan ustedes de la falta de medidas de un régimen sancionador de medidas ejecutivas

pero se han dado cuenta ustedes de que esta ley iba dirigida únicamente a las administraciones públicas dudan ustedes de la seriedad y el rigor de las distintas administraciones dudan ustedes de la capacidad de control de los plenos de los ayuntamientos

a las diferentes diputaciones a nosotros sinceramente esta medida nos parecía fuera de lugar

nosotros confiamos en la capacidad de control de las juntas generales y de los plenos municipales

hemos vuelto hacer los deberes y como a través de las enmiendas parciales incorporaremos al mundo privado en el objeto de la ley también trataremos de incluir el correspondiente régimen sancionador aunque nuestro principal escenario de trabajo siga siendo el basado en la concienciación y en la formación en caso contrario es difícil cambiar los parámetros a los que aspiramos si realmente aspiramos a una transición energética

en la línea que comentamos así que ya ven lo que echaban de menos ya está

también yo sinceramente y después de oír sus palabras más espero que salvado este trámite de hoy

dejen ustedes de lado los mensajes para la galería y participen en la mejora de esta ley para que entre todos y todas podamos

energética es bien importante en la dirección que como pueblo debemos tomar

que la transición energética que viene nos pone ante una encrucijada

que la energía que no se usa es la que menos contamina aquí pasa algo parecido las enmiendas de totalidad que menos contaminan un debate son aquellas que no se presentan por eso nosotros hoy votaremos no a la suya

y seguiremos intentando como digo llegar al mayor consenso con ustedes y con el resto de los grupos eskerrik asko

qué pícaro señor grajales con el gas de kilómetro cero ahí me ha dado un golpe

con lo de los sesenta y seis trabajadores del eve y tal igual ha habido un malentendido yo lo que quiero decir es que

si este asunto es prioritario para esta comunidad yo lo que entiendo es que hay que tender hacer un empuje y una solución pública colectiva etcétera etcétera

es que la energía está en manos de empresas normalmente empresas muy grandes que tienen mucho poder que el ministro soria

tuvo que dimitir reconoció que le mandaban los decretos escritos entonces nosotros lo que décimos es que

y hacia el control público de la energía y que estén menos orientadas hacia el mercado son importantes porque el mercado te va a estar dando unas señales normalmente a bastante corto plazo

son retos a más medio o largo plazo aunque ya empiezan a ser a corto entonces por ahí es por donde va el asunto en este sentido un eve fuerte un eve que tenga

que tengas cientos o miles de trabajadores unas agencias públicas de energía

usted decía que la ley es posible y es oportuna nosotros décimos e insistimos en que es insuficiente prácticamente se va a quedar afectando a ese tres por ciento

por parte del resto de grupos uno de los problemas que yo más me temía que es

todavía lo envolvemos más parece que se está consiguiendo más parece que

cuando en realidad todos sabemos sinceramente que en lo global no es un avance nosotros por eso decíamos que tenemos más de dos años de legislatura y tiene que venir la ley de cambio climático

de hacer las cosas como entiendo que hay que hacer y después venir con las dos leyes conjuntas a final de legislatura pero bueno

podemosi buruz yo he reconocido que hace falta una ley evidentemente y usted también lo cree compartimos muchas cosas pero claro el problema es que no es esta la ley

el único ámbito al que hay que dirigirse con la ley y tenemos este problema que este gobierno después de que en

en la legislatura anterior la única ley sobre energía que se presentó fue la ley antifracking que vino desde la calle y ahora pasamos después de dos legislatura una ley que solamente afecta al tres por ciento del consumo y alguna pincelada por ahí entonces claro usted dice usted es tan constructivo y ha presentado setenta y siete enmiendas

o sea no se trata de eso no se trata de eso se trata de decidir en una enmienda a la totalidad

y yo insisto en que es urgente

ha mencionado algo acerca de la agencia internacional de la energía en su outlook de dos mil diecisiete publicó hace no mucho lo que nos está diciendo es que las políticas bau business as usual negocios como siempre bueno directamente nos matan a todos las new politics escenario

alguna mejora y lo dice claramente dice es insuficiente para los objetivos de cambio climático lo que necesitamos son políticas mucho más

y ahí es donde no está entrando esta ley por eso tenemos problemas con esto

estamos mirando las moscas y tenemos elefantes en la sala evidentemente

uno de los problemas uno de los mayores problemas en la energía es que decide madrid

generales las saca madrid y las infraestructuras las decide madrid

una política energética soberana que nos lleve a una soberanía energética

en lo que no estoy tan de acuerdo es en lo mucho que usted dice que ha mejorado la situación usted dice el eve está desde el ochenta y dos tal el petróleo en el mix pero no es solo un problema de valores relativos es un problema de valores absolutos y lo decía antes o sea

el año que más petróleo hemos consumido en la historia de este país el que más claro quiero decir que la geología no entiende tanto de mixes

entonces si el año pasado fue el que más consumimos es en el que más problemas tenemos con respecto a la sostenibilidad

eso sino que el eve tiene otro gran problema que ha centrado demasiado a mi entender acorde con la mentalidad de este gobierno

en el vuelco hacia el gas y es algo que aquí no está cuestionado el tema del gas

y las estrategias también las del dos mil once que aprobó el gobierno lópez

y el objetivo era que subiera hasta un cuarenta y nueve por ciento el consumo del gas

fíjense que dicen que los sucesivos gobiernos han tomado cartas en el asunto pues resulta que estamos en un cuarenta y siete por ciento de consumo final de petróleo y un treinta y dos por ciento del gas tela

es que la realidad no coincide en casi nada con los planes

es un poco difícil yo aquí lo que pido y que veo que no es lo que se va a hacer es hacer un debate sincero por eso digo que no es tanto criticar

aquí cuando se viene y se dice es que se habla para la galería y quién no habla para la galería arantxa también no ha hablado para la galería

y todos lo mismo aquí para la galería hablamos todos otra cosa es demagogia porque demagogia para mí demagogia es y en este caso no es su departamento demagogia es

no sé cuántos y decir que euskadi es un emisor pequeño de gases de efecto invernadero

porque emite solamente el cero coma cinco por ciento de la unión europea

y resulta que no somos el cero coma cinco por ciento resulta que somos el cero coma cuatro por ciento de la población europea claro somos un emisor pequeño o somos un emisor grande somos un emisor grande porque lo que importa es per cápita

somos un gran emisor como una sociedad con un peso industrial

del veinticuatro por ciento o no sé dónde anda somos un gran emisor

al dos mil cincuenta que va a ser muy difícil pero inmediatamente después décimos política gas dos mil cien

y aquí es ya donde yo me pongo de los nervios porque resulta que el demagogo soy yo vamos a ver

si no lo explico reviento esto yo creo que es urkullu usted que dice que es gasista yo creo que

los recursos los recursos que quedan de gas en el mundo vale entre cuatro países

tienen el cincuenta y siete coma siete por ciento de las reservas mundiales de gas vale y entre doce países

los ciento noventa y cuatro países restantes tienen menos gas que irán o que rusia tela de dependencia geopolítica tela de dependencia geopolítica pero no solo eso sino que según

tenemos gas a consumo de hoy para cincuenta y uno años

más quince que se lanza el plan cuántos son sesenta y pico y nosotros vamos a estar usando gas hasta el año dos mil cien y yo soy el demagogo

porque el consumo del gas ha ido aumentando a un dos coma cinco por ciento en los últimos veinticinco años

va a seguir aumentando a un dos por ciento no va a aumentar aquí no va a aumentar aquí

y va a aumentar mucho en otros sitios con lo cual

se quedan de cincuenta y uno años que se supone que hay ahora se quedan entre treinta y dos treinta y cinco dependiendo un poquito de alguna cosa treinta y dos treinta y cinco

que no que no que la estamos liando que la estamos liando es decir claro que vamos a tener que depender del gas igual que treinta y dos o treinta y seis años después de que se creara el eve seguimos dependiendo en un cuarenta y siete por ciento del petróleo

otra cosa es decir políticas pro y para que se aumente el consumo de gas son mejores y eso es lo que se está diciendo y la ley no se mete

para nada con todo esto y claro demagogia no sé pero hacernos trampas al solitario nos hacemos unas cuantas yo

no va a salir pero creo que estamos hurtando hurtando a la sociedad el debate profundo de los cambios profundos

sacará su informe en otoño y dirá que la situación es crítica ya lo ha filtrado la situación es crítica

no se le puede decir que ahora somos sostenibles energéticamente porque por fin hemos conseguido una ley que pone en marcha no sé cuántos y que después pueden venir otras amaitu mesedez creo que hace falta un poco más

señor otero y mira que yo venía hoy conciliadora he medido el tono he medido todo es que dice unas cosas

nada lo que pasa es que a ustedes cuando les interesa quieren abrir un proceso participativo

fuéramos una asamblea es que no es que la forma de gestionar leyes de hacerlas

es que no cuadra una cosa con la otra y usted empezaba diciendo

un empuje público colectivo algo así ha dicho y entonces yo le digo pero es prioritario o no es prioritario y mientras hacemos esas asambleas con esa cantidad de gente y le preguntamos a todo el mundo para no hurtar la participación de la sociedad qué hacemos

los datos del petróleo es que es cuando más se ha consumido hay que acabar con el consumo de los combustibles fósiles

y entre dejar de consumir petróleo y llegar a las renovables qué hacemos soplar soplar utilizamos un fuelle cogemos velas qué hacemos

por eso se llama transición energética para ir de aquí a aquí hay que recorrer algo en el medio

porque yo venía muy conciliadora han bloqueado y boicoteado muchas medidas

y el gas durante un montón de años en este parlamento que quizás

y usted lo sabe y trae aquí la estrategia energética que aprobó el gobierno de lópez estrategia energética aprobada por unanimidad en la que todos los partidos políticos propusieron lo que entendían en forma de instrucciones políticas y que fuera alabada por todos los grupos políticos ahora

y usted pregunta es la ley que hace falta yo le preguntaría hace falta la ley hace falta es prioritaria urge la necesitamos

en su primera intervención para trabajar entre todos y de una forma constructiva ser capaces de plantear negociar y acordar el camino que tiene que seguir euskadi en el tema energético porque aunque a usted no le guste que ya sé que no y puede que a mí tampoco

es la que es por tanto no podemos inventarnos un ordenamiento jurídico vasco al margen del ordenamiento jurídico general y usted lo sabe

pero es que es el que es por eso tenemos que construir leyes dentro de lo que podemos hacer decide madrid en lo que tiene que decidir madrid

para llegar al mejor escenario posible y usted hablaba de que era necesario hacer un análisis sincero más que sincero objetivo

porque es el que tiene los datos el que tiene los datos de emisiones el que tiene los datos de lo que supone el transporte de mercancías lo que supone el gasto y demanda de las industrias no es sincero es objetivo

porque es a eso a lo que tenemos que responder es lo que entiendo yo y le podría decir un montón de cosas pero por defender uno de los departamentos que lleva el gobierno socialista

declaraciones que había hecho la señora elena moreno viceconsejera de medioambiente en una de las cumbres en las que se habló

es que está muy bien esto de que hoy toque compararse con la renta per cápita

no claro es que somos más emitimos porque claro depende con quién nos comparemos ya pero es que eh bildu utiliza la comparativa depende en qué tema

hemos dicho que hay que compararse con regiones porque euskadi es lo que es en otros momentos eh bildu

con países estados porque interesa o aquí elegimos

porque es lo que le interesa para que salga la suma o la resta de lo que quiere decir por tanto termino aquí ni trampas

ni se ha hurtado a nadie nada porque usted va a tener oportunidad de debatir qué representa a una parte de la sociedad vasca que es la que le ha votado

ni falta de sinceridad ni nada aquí hay objetividad datos concretos ganas de que haya una ley necesaria prioritaria

pues somos capaces de no boicotear todo lo que sale en el medio eskerrik asko rojo

yo señora rojo sí creo en los procesos participativos ciudadanos y

y si podemos hacer un proceso participativo para el nuevo estatuto y su grupo lo comparte pues también lo podremos hacer para la ley de cambio climático

donde están ustedes pero bueno esta no es la cuestión ahora mismo otero jaunak diagnostiko zuzena egin du nire ustez

garatzeko tresnak noren esku daude gehienak estatuaren esku las competencias para desarrollar las renovables la mayor parte de ellas están en manos del estado las primas de las renovables los derechos de las personas usuarias las autorizaciones de las instalaciones el autoconsumo

promover como quisiéramos las energías renovables entonces cuál es la situación que tenemos que la otra pata de la transición energética que es el ahorro y la eficiencia sí tenemos competencias

en ese proceso viene esta ley y es una ley insuficiente pero es la que tenemos ahora mismo es la que tenemos no estamos en el gobierno no proponemos el calendario legislativo y por lo tanto me parece precipitado hablar de cheques en blanco porque estamos al inicio de la tramitación

enmiendas que ya se han hecho tendríamos que en seis meses todas las administraciones tienen que tener inventariados sus consumos en un año tienen que tener todas las administraciones planes actuación energética en dos años tienen que tener todas ellas las auditorías energéticas hechas en cinco años todos los edificios del país tienen que tener sus certificados de eficiencia energética

en ocho años se tiene que dejar de utilizar gasoil en la calefacción

bueno usted ha hablado del pico de dependencia del petróleo tenemos un paso ahí

se puede mejorar y lo ideal es que durante la tramitación de la ley con sus enmiendas y con las de todos los grupos lo podamos hacer ha dicho que la ley no es ambiciosa y yo estoy de acuerdo que puede ser más ambiciosa pero claro ha hablado del gobierno de baleares

de la consejera socialista sabe usted quién es el director de energía y cambio climático en el gobierno de baleares

del partido verde equo ahí está la ambición claro

comparar a dos gobiernos que ideológicamente son diferentes qué han hecho por el ahorro y la eficiencia energética

vascos históricamente pues muy poco pero la situación que tenemos es esperamos otros dos o cuatro años el ipcc lo ha dicho claramente tenemos que actuar ya por lo tanto usted ha dicho esta ley no es un gran avance no pero es un avance es un avance y lo que no podemos hacer es dar mensajes contradictorios necesitamos este avance no es suficiente pero lo necesitamos gracias

insisto en que usted pretende deliberadamente confundir la parte por el todo se olvida usted además de que generalmente cuando las cuestiones se plantean en el entorno de o todo o nada

a la nada esperemos que en este caso no sea así yo estoy convencido de que en la ponencia todos sabremos dar lo mejor de nosotros mismos para sacar esta ley con el máximo de apoyos

en una única ley que reúna toda la lucha vasca contra el cambio climático como si la lucha contra el cambio climático empezase ahora o la transición energética empezase ahora y en este país contra el cambio climático se viene luchando hace muchos años como le decía

suele nombrar por cachos pero en este país hace muchos años ya que empezamos con estrategias de desarrollo sostenible con modificaciones

con planes directores de movilidad sostenible con planes directores de vivienda con programas marcos ambientales con el plan mugarri en araba

con el programa bizkaia veintiuno en bizkaia con la agenda veintiuno local en todos los ayuntamientos en fin que esto no ha empezado hoy

que casi todos los partidos que tenemos representación en esta cámara

dice usted que la geología no entiende de mixes es verdad pero la sociedad

se lo he dicho esta sociedad consume intensivamente y eso es lo que tenemos que situar

le he dicho antes este cambio puede y debe producirse mientras se mantiene un coste razonable de la energía para los usuarios y se garantiza en todo momento

y además creemos que las políticas sobre el mix de generación requieren mantener todas las opciones abiertas mientras las nuevas tecnologías

no ha sido objeto de crítica en su enmienda a la totalidad y que por lo tanto hoy quizás no tocaba hablar de esto pero como se ha mencionado varias veces

o que solo pretende obtener gas de kilómetro cero

le voy a decir mire el eve en relación con las energías renovables se dedica a la fotovoltaica a la biomasa

en relación con la eficiencia energética promueve actuaciones de mejora energética próximamente publicará convocatorias para ayudas a la eficiencia energética en industria en polígonos industriales en sector terciario y en el sector de la administración pública local

certificación energética de edificios ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y edificios públicos etcétera etcétera en el sector del transporte

participación en el desarrollo de infraestructuras de recarga pública en colaboración con los ayuntamientos ayudas en inversiones de transporte y movilidad eficiente y en relación con la digitalización de la energía bidelek cuatro punto cero

yo creo que ya tienen labor más allá del gas que por otra parte también es necesario espero que nos veamos en la ponencia con esta buena disposición
y mientras tanto les deseo un buen día a todos y a todas gero arte eskerrik asko grajales jauna

el proyecto de ley de sostenibilidad energética para la comunidad autónoma vasca que tiene por objeto establecer los pilares normativos de sostenibilidad energética

porque tenemos un cumplimiento que debemos plasmar en la normativa de la comunidad autónoma vasca que es la directiva europea treinta y uno barra dos mil diez relativa a la eficiencia energética de los edificios que obliga a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte

siendo obligatorio para los edificios de las administraciones a partir del treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho esta es la obligación este es este es el ámbito por qué porque había una obligación de cumplir una directiva europea ahora se inventan loas este era el ámbito el objetivo y ahí estamos compartimos

lo dijimos en la presentación del proyecto se ha perdido una gran oportunidad hacer un proyecto de ley no solo para los edificios de las administraciones vascas

renovables y del ahorro y de la eficiencia energética en el país vasco

promoción de las energías renovables un debate que este gobierno

no quiere ese debate y por eso no se plasma en ninguna de este gobierno un proyecto de ley que estamos debatiendo una enmienda a la totalidad

otra enmienda a la totalidad porque si vamos al artículo ciento treinta y cinco dice que serán enmiendas de totalidad las que postulen su devolución al gobierno o las que propongan un texto alternativo al gobierno las enmiendas que ha presentado el grupo nacionalistas vascos socialista vascos de hecho

no han hecho ninguna mención pero de hecho es una enmienda a la totalidad

las enmiendas del grupo nacionalistas vasco y socialistas se modifica la exposición de motivos

pasa de veintiocho artículos a sesenta y ocho tres disposiciones adicionales cinco disposiciones finales señora rojo

válido clásico de un proyecto de ley que venga dios y lo vea yo llevo aquí unos años y no lo había visto nunca y todo esto

quede excluida de la aplicación de esta ley porque además de traer estas enmiendas lo que nos ha traído es la ponencia hecha

que la tiene hecha qué ponencia me habla de qué ponencia me está hablando de la que ya han hecho han hecho la ponencia luego las enmiendas y luego venimos a aquí en eso estamos

mire y otra cosa que dice la ley
que este parlamento queda excluido de la ley de eficiencia energética lópez de ocariz andrea es explicación de voto esta cámara

mesedez que es una explicación de voto si me

que no le había dicho nada mesedez que es una explicación de voto

porque efectivamente no compartiendo que es obligatorio hacer esta ley

tiene mucho sentido común y compartimos muchos de sus argumentos pero le digo que además de esa enmienda hay otra a ustedes le parecerá bien o no lo que he dicho pero hay otra que de derecho han dicho ustedes que no pero de hecho la hay y ahí está y

a sesenta y ocho pues no es lo más normal verdad entiendo yo entiendo yo y les digo esta cámara queda excluida

esto no es un edificio de administración pública donde redactamos las leyes cuál es el argumento para que esta cámara no tenga esa aplicación ni el ararteko ni el tribunal vasco de cuentas no son edificios de la administración pública vasca no son pues esta cámara sí que necesita algunas medidas de eficiencia energética bastantes medidas de eficiencia energética y aquí estamos oiga aquí estamos y no nos ponemos colorados o sea

es que es sorprendente señorías sorprendente mire

que vamos a aplicar ambicioso si somos ambiciosos o no yo les voy a remitir a una respuesta que nos dio la señora consejera en su día cuando la decíamos que no íbamos a cumplir los objetivos los objetivos que
se han acordado en parís los objetivos que cómo tenemos como administración amaitu mesedez lópez de ocariz andrea sí señora me va a permitir un minuto amaitu mesedez

no tenemos que cumplir los objetivos quien cumple los objetivos son los estados miembros nosotros no no somos

todo el espíritu independentista se lo ha cargado en un minuto

y por decir también el gobierno de españa señor otero el gobierno de españa está elaborando una ley de cambio climático y transición energética también ha hecho un comité de expertos también ha hecho una exposición pública previa para recoger el criterio porque es básico aquí no aquí es el modelo

o tragamos o nada muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

bizitza baldintza duinak bermatzen dituen sistema la semana pasada los y las pensionistas de este país salieron masivamente a la calle para defender su derecho

porque hoy son ellos pero mañana seremos otras

como gritaban por las calles de nuestras ciudades nuestros mayores

nos contaban el hastío por los empleos precarios de sus hijos e hijas por el desempleo que han convertido a las pensiones en sustento principal de muchas familias en nuestro país nos hablaban de su cabrero por el prepago farmacéutico y por todas esas medicinas que han quedado fuera del sistema y que tienen que pagar y nos hablaban también

por las subidas del precio de la energía por ejemplo que abocan a muchos pensionistas a elegir entre calentarse y comer esto lo decían ellos en las calles y antes una subido pírrica del cero coma veinticinco que es insultante los y las

y dignas las pensiones son un derecho no una limosna gritaban

esa reivindicación sin ambages porque como decía hace quince días aquí estamos hablando de una cuestión capital una cuestión capital para cualquier sociedad que aspira a tener un estado del bienestar desarrollado que aspira a garantizar una vida digna a su ciudadanía de toda su vida y a la vista está que no se puede demorar más

que traemos el tema de las pensiones y de la transferencia de la seguridad social a esta cámara ya lo hicimos la legislatura pasada y en esta misma también ya son varias las iniciativas sobre el tema que hemos traído desde eh bildu porque es algo que nos preocupa y es algo que nos porque en ese trabajo continuo por vertebrar un sistema de protección social completo y propio la seguridad social y por ende la gestión sobre las pensiones es un tema

eta guk ez dugu hori nahi euskal gizartearentzat miren ante las protestas masivas de los y las pensionistas la respuesta del partido popular ha sido decir que los pensionistas no han sido el sector más perjudicado por la crisis incluso que han ganado

respuestas en mi humilde opinión respuestas a la defensiva de un partido que modificó la ley de pensiones en el dos mil trece sin consenso sin consenso

lleva tiempo atascada sin dar respuesta alguna a una cuestión vital y mientras el sistema estatal señorías hace aguas

únicamente dirigidas a reducir el gasto es decir a reducir las pensiones mientras por otro lado con sus reformas laborales

fruto de cotizaciones cada vez más exiguas consecuencia de un mercado laboral precarizado y de imputar al sistema

que nadie todavía ha probado que generen empleo de calidad

millónes de euros de déficit con un saldo en el fondo de reserva de apenas

con una deuda de casi veintisiete mil quinientos millónes de euros

de los que casi cinco cobran pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional en definitiva un sistema que necesita cambios urgentes y esos cambios lamentablemente no los podemos decidir en esta cámara

ere bermatua y ante esta situación treinta y ocho años después seguimos sin tener transferidas las competencias sobre la seguridad social que prevé el estatuto treinta y ocho años después aquí seguimos sin ninguna de las competencias

insuficiente unas competencias que dotarían a nuestro sistema de protección social de herramientas para responder a la ciudadanía vasca de mejor manera de una manera

asumir sin demora unas competencias que desde los sucesivos gobiernos del estado se han negado a transferir aduciendo para ello argumentos ad hoc utilizando el déficit del sistema en nuestra comunidad autónoma como excusa cuando es sabido que el déficit es del sistema estatal en sí o invocando a la caja única como si fuera el santo grial al parecer

sabemos que no es de la misma manera que nosotras y me atrevería a decir que tampoco es de la misma manera que el partido nacionalista vasco me gustaría saber en este caso qué dice el partido socialista obrero español

porque ha estado en la moncloa muchos años y se ha negado sistemáticamente a la transferencia de la seguridad social desde euskal herria bildu creemos firmemente

sería un gran paso para el bienestar de la ciudadanía vasca pero no tenemos ninguna duda que es un paso hacia un sistema propio que es

desde nuestra coalición elkarrekin podemos traemos hoy también una iniciativa una proposición no de ley cuyo objetivo era y es que el parlamento vasco se posicione claramente a favor de una serie de reformas que garanticen un sistema público de pensiones basado en la solidaridad

entre territorios y que sea pilar de una sociedad con condiciones de vida dignas es decir proponemos medidas concretas que garanticen unas pensiones públicas dignas y hemos llegado a un acuerdo

de transacción que creemos que va a posibilitar esto de una manera potente sabemos que el gobierno del partido popular en madrid hará caso omiso a estas propuestas no esperamos

no esperamos menos de un partido popular que responde con insultos y menosprecio a todos aquellos y aquellas pensionistas que se están movilizando de nuestras pensiones públicas pero más allá de la consabida respuesta del partido popular lo que queríamos hoy con esta iniciativa es que el parlamento vasco se posicione como expresión mayoritaria de la sociedad vasca a favor de una serie medidas

el ataque que nuestro sistema público está sufriendo un ataque por parte de intereses privados que buscan devaluar las pensiones públicas desde hace tiempo para ampliar el mercado de las pensiones privadas de capitalización

que pretende extender las pensiones privadas a costa de las públicas se trata de posicionarnos a favor de un modelo de reparto solidario organizado desde lo público

tienen como uno de sus objetivos convertir este sistema de pensiones en un sistema raquítico con el objetivo de que las personas necesitemos completar las pensiones para tener una jubilación digna complementar las pensiones con productos privados que se encargan de recomendarnos algunos ministros con más

alguna dirigente del partido popular que ya ha sido mencionada anteriormente

para nuestra pensión después de decir además que hay pensionistas que están más años viviendo de la pensión que de su trabajo hay personas que además de ser de derechas son unas auténticas impresentables ese modelo que nos están intentando imponer es el modelo impulsado por organismos internacionales al servicio del capital el modelo más abiertamente neoliberal que se intenta importar a nuestras pensiones y que ya ha sido impuesto en algunos países incluso a sangre y fuego

tenemos claras las principales medidas necesarias para derrotar y tumbar ese modelo que es impulsado sobre todo por el partido popular pero al que no se le hizo frente desgraciadamente tampoco desde el último gobierno socialista que hubo en el estado

porque creemos que estamos a tiempo de darle la vuelta a este ataque y garantizar un sistema de pensiones digno suficiente y solidario y nuestro grupo

a hacerla sin ningún tipo de sectarismo nosotras compartimos la preocupación por la situación del sistema público de pensiones

y que por lo tanto debemos potenciar sistemas privados complementarios de capitalización no lo aceptamos porque creemos que ese es el objetivo aunque inconfeso

y tampoco aceptamos que el problema del déficit del sistema se deba a la pirámide poblacional la pirámide poblacional influye pero no es la que está haciendo

que quieren que nos traguemos para ir implementando medidas varias incluido el retraso en la edad de jubilación el problema en nuestra opinión es fundamentalmente de cotizaciones no tanto de número de cotizantes versus pensionistas el problema es de falta de ingresos económicos al sistema

para nosotros por lo tanto el sistema público de pensiones además de necesario es viable si hay voluntad política para ello no vamos a negar desde nuestra coalición

influye el alto desempleo porque influye y mucho pero sobre todo creemos que influyen también las bajas cotizaciones

las que han contribuido precisamente a debilitarlo de manera intencionada y recalco lo intencionada las reformas laborales y la reforma del propio sistema de pensiones han venido a posibilitar el gobierno del partido popular ha implementado esas medidas para debilitar el sistema en vez de aplicar las medidas que lo puedan potenciar muchas de ellas son las que se incluyen en la transacción que hemos acordado hoy tras la reforma laboral del año dos mil diez

la que de manera especial trajo como consecuencia no solo altos niveles de paro sino bajos salarios precariedad laboral masiva y contratación abusiva contribuyendo decisivamente al déficit de la seguridad social las cotizaciones

y el gobierno en vez de afrontar la situación escuchando las propuestas de la izquierda y de los sindicatos para reforzar el sistema público

al fondo de reserva hasta dejarlo exhausto y casi agotado para ello no han dudado en hacer reformas legislativas que le permitan la utilización de ese fondo de reserva

tenemos que blindar el fondo de reserva de las garras del partido popular que lo utiliza para no afrontar los cambios necesarios que garanticen la suficiencia del sistema claro que sí

junto a ello y también para evitar afrontar los cambios necesarios que están incluidos en la iniciativa que aprobaremos hoy no dudaron en aprobar una reforma del sistema de pensiones pasándose como ya dije en esta tribuna en una ocasión el pacto de toledo por el arco

una reforma la ley veintitrés barra dos mil trece reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones hecha de manera expresa para conseguir que las pensiones tengan subidas paupérrimas

para convertirlas de esta manera en insuficientes para el sostenimiento de la vida de las y los pensionistas además esto se hizo bajo el argumento demagógico de que así se garantizaría la sostenibilidad del sistema y se garantizarían las subidas de las pensiones lo que en la práctica está siendo el famoso e infame cero coma veinticinco

que saben perfectamente que lo único que ha supuesto ha sido un empobrecimiento general de las pensiones pero también

en la seguridad social han contribuido algunas medidas de los gobiernos en forma de ventajas al empresariado bonificaciones en las cotizaciones tarifas planas etcétera

que nosotros creemos que hay que eliminar medidas que se venden políticamente como ayudas a la contratación pero cuyos recursos curiosamente no salen de los presupuestos

debemos por lo tanto en nuestra opinión acabar con estos regalos a las empresas a cargo del sistema junto a ello desde nuestro grupo proponemos también que los gastos administrativos de la seguridad social sean financiados directamente por los presupuestos generales

lo cual libraría una cantidad importante de dinero del sistema con el que actualmente se sufragan estos gastos y nosotros incluiríamos algunas medidas más que no se incluyen en la transacción final porque no son compartidas

los grupos con los que hemos llegado a un acuerdo pero yo las voy a mencionar porque nos parecen que son positivas pensamos hay que incidir en los ingresos pensamos que hay que destopar las bases máximas de cotización esta medida permitiría un ingreso de ocho mil millónes al año al sistema de seguridad social

al sistema y por supuesto nosotros somos partidarios de la eliminación total de las medidas de bonificación fiscal a la contratación de planes de pensiones privados

pensamos y esto sí va en lo que va a aprobar hoy este parlamento que hay que incidir de manera decisiva en el aumento de los ingresos en lo más inmediato en lo más urgente

puedan ser cubiertos por los presupuestos generales del estado porque para otras cosas ya hay dinero y en segundo lugar y a medio plazo conquistando una nueva normativa laboral

y por lo tanto con buenas cotizaciones y esto pasa en primer lugar por derogar la reforma laboral del partido popular del año dos mil doce

nuestros pensionistas saben ustedes están en pie de guerra defendiendo un sistema público de pensiones que nos garantice una jubilación digna

vamos a seguir peleando por la defensa de un sistema público de pensiones digno para todas y todos lo haremos en las calles y lo haremos en los parlamentos

creemos que lo hemos conseguido y estamos satisfechos sabemos que falta muchísimo por hacer y que desde luego el partido popular no comparte esta exposición que yo he hecho

presidenta en el día de hoy es posible que muchos vengamos aquí hoy con recados de nuestros mayores más próximos y es seguro que una cosa podrá compartir todos ellos y todas ellas no podemos permitir que se desmantele

que quienes nos precedieron supieron levantar no lo queremos aceptar ni por los pensionistas actuales ni por los que vengan detrás

y constatamos afortunadamente una amplia voluntad en esta cámara a favor del sistema público y constatamos un amplio acuerdo sobre las medidas a adoptar para consolidarlo incluso con los matices que podamos introducir unos y otros grupos ese es el mensaje principal que nos vale a los socialistas

de una forma tan ejemplar tan masiva y tan clara tenemos propuestas para afianzar un modelo público que garantice ingresos dignos y que no se pierda poder adquisitivo

y cuando estamos poniendo sobre la mesa medidas realistas lo que queremos decir es que no hay excusas para no hacerlo ni la durísima crisis padecida ni el envejecimiento de la población ni las obligaciones contraídas con europa para el cumplimiento del déficit que son realidades

pueden ser la excusa de un gobierno mal acostumbrado a echar balones fuera para ocultar su incapacidad de gestionar un país lo que está ocurriendo con el sistema de pensiones

un paso más en el plan diseñado para desmontar una a una todas las piezas del estado de bienestar y de los derechos sociales conquistados con sus imperfecciones seguro pero con un indudable progreso y cohesión seis años de gobierno de rajoy dejan como balance provisional más desigualdad y más desprotección dejan un rastro de medicamentazo que ha llevado a las personas enfermas

son precisamente los más mayores quienes cobran pensión a renunciar o incluso a reducir los fármacos que le recetan sus médicos y que en euskadi hemos podido revertir gracias a la compensación que hemos arbitrado dejan un rastro de empobrecimiento de las familias que en muchísimas ocasiones

que desde la reforma laboral del dos mil doce ha sufrido un claro deterioro de sus salarios

las actuales pensiones y para asegurar las futuras de la población activa y un vaciamiento absoluto de la hucha que pretendía atender situaciones puntuales de insuficiencia

que han alertado de esta situación de ese incremento de las desigualdades

sobre los incrementos salariales sobre el sistema de salud sobre la necesidad de garantizar un sistema público ese es el legado señores del pp es conocido es público

que tuvieran que volver a hacerlo a quienes hace cuatro décadas ya hicieron todo el esfuerzo que les correspondió el de luchar por el sistema público el de trabajar y el de cotizar cuando tenían sus derechos bien ganados este gobierno les ha obligado a levantar la voz y el gobierno les dice que no molesten que ya les suben un euro al mes cada año

lo que dicen los pensionistas y lo que décimos una gran mayoría de esta cámara incluso con nuestras diferencias

incremento de las pensiones en función del precio real de la vida

según el ipc no estamos hablando de caridad que se dispensa al gusto del gobierno de turno es un derecho el que tienen los pensionistas en el resto de europa

y el que garantiza el artículo cincuenta de nuestra constitución a la que rajoy invoca cuando acusa a otros de incumplir la ley y se puede hacer es obligado que se haga porque como décimos es un derecho que el gobierno está forzado a atender y probablemente quiera dar pasos para hacerlo supongo que no serán las

de más enjundia y en este pleno como en el congreso y en contra de los argumentos escapistas del gobierno estamos proponiendo medidas concretas que financian esa actualización derogar el factor de sostenibilidad impuesto por la mayoría absoluta que ya no tiene rajoy

que empobrece cada día a más de ocho millónes de pensionistas

la hucha de las pensiones eliminar los gastos burocráticos y administrativos de la cuenta de las pensiones las cotizaciones actuales se deben destinar a cubrir las pensiones

que se deberán cargar a la cuenta de los presupuestos generales hay que recuperar el pacto de toledo ese que ustedes ignoraron cuando pusieron en marcha el factor de sostenibilidad

incluido el destope de las cotizaciones máximas o el estudio de nuevas figuras impositivas cada cual podrá tener una opinión pero es ineludible ese debate y la necesidad de ese acuerdo y hay que actuar en lo inmediato estableciendo las referencias al ipc

y hay que actuar en el mercado laboral hay que actuar ya recuperando la negociación colectiva esa que derogó por decreto hace seis años este gobierno como eje para una recuperación salarial

hay que acordar un nuevo estatuto que recupere esos derechos perdidos y los actualice mirando a las nuevas realidades profesionales y hay que hacerlo como estamos haciendo aquí

contra situaciones que eluden las cotizaciones que realmente corresponden a los trabajadores y muy especialmente a las trabajadoras y para mejorar esas herramientas propias

que el gobierno de rajoy se siente de una vez con el gobierno vasco para acordar lo que dice el estatuto el traspaso del régimen económico de la seguridad social para que contemos

que aunque pueda parecer menor es esencial para combatir la brecha salarial por género y la brecha generacional por pensión quizás haya quien tenga ideas mejores

ni echarles en cara que en los peores tiempos de la crisis a ellos finalmente no se les despidió del sistema el pp es especialista en confrontar

en otras materias y ahora pretende confrontar a pensionistas con desempleados o con precariados y demuestra como mínimo que definitivamente

desconocen el país que gobiernan que está incapacitado para gestionarlo y que lo único que hace es que los pensionistas a día de hoy se sientan insultados por ustedes

creo que este debate ha superado o ha evolucionado sobre el debate que tuvimos el pasado dos de noviembre y hoy hemos avanzado gracias al trabajo de la mayor parte de esta cámara y yo creo

y sinceramente creo que en base también al realizado en la enmienda que nosotros presentábamos un trabajo que fundamentalmente traía

el debate del cómo el debate de los retos de los problemas del sistema que hay superar y el debate de dónde el debate de la transferencia el debate de la competencia

desde su atalaya hoy y seguramente nos deleitará

con algunos planteamientos que ya ha utilizado en lo referido al debate del cómo

de los problemas del sistema de los retos del sistema pues ya nos contará su titularidad como salvadores del sistema como efectivos creadores del fondo de reserva hoy ya con menos

seguramente nos contará cómo rajoy hoy ha convocado un pleno monográfico sobre pensiones

al ámbito de las competencias seguramente nos hablará de ese miedo deficitario aquí

y también nos hablará de su teoría de la mercancía averiada esperamos hoy señor damborenea algo más algo más que esto principios

basado en la existencia de unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia con unas fuentes de financiación ciertas

los pensionistas unas pensiones predecibles y adecuadas para nosotros el sistema de seguridad social debe contribuir a una serie de objetivos sociales de primer orden

mantener su carácter público tanto en su financiación como en su gestión velar porque las personas mayores no estén

por ello la seguridad social debe reconocer unas pensiones mínimas suficientes e irregresivas y que deben ser actualizadas atendiendo

ser predecible tiene que ser un sistema predecible evitando factores correctores de evolución incierta y en todo caso reductora de pensiones y debe promover la solidaridad son los principios

los retos del sistema somos conscientes de que el sistema se enfrenta a retos que el sistema genere soluciones de adaptación a esos retos exige realizar una exhaustiva

todos sabemos de la complejidad política de esa previsión pero si no se realiza si no se actúa si se deja pasar el tiempo esperando a que el problema desaparezca o el reto disminuya las consecuencias serán graves no hay tiempo que perder porque los retos no van a desaparecer sin más puede

encontramos multitud de definiciones determinaciones elementos tasas de natalidad mortalidad tasa de dependencia

cantidad de ratios diferentes magnitudes y sus correspondientes escenarios evoluciones y desviaciones si tuviesemos que sintetizar

el reto demográfico y el reto del empleo de calidad y cómo se ha enfrentado a estos retos el gobierno del estado y fundamentalmente desde diciembre del dos mil once la décimo legislatura la de la mayoría absoluta del gobierno de rajoy pues

retos primero una falta absoluta de consenso mayoría absoluta sí

al manejo de las pensiones en sus maniobras dentro del sistema la ley veintitrés barra dos mil trece está clara

y también una falta de transparencia en la información hacia la ciudadanía señor damborenea qué nos va a decir de la carta naranja aquella que ustedes comprometían donde iban a dar a cada pensionista esa información además de un incumplimiento de la ley por ejemplo la ley orgánica la tres barra mil novecientos setenta y nueve nuestro estatuto y qué resultados qué medidas

ha puesto en marcha el gobierno del partido popular para enfrentarse a los principales retos del sistema de pensiones hay alguna medida en el ámbito del reto demográfico cero conjunto vacio en el otro ámbito reforma laboral del dos mil doce

buena acción orientada a generar empleo de calidad sin duda esto es ironía un paréntesis otra medida la ley

ejemplo de regresividad y falta de transparencia en estado puro

ley el veintiocho barra dos mil doce sobre la libre disposición del fondo de reserva la más absoluta de las improvisaciones

nosotros hemos hecho un planteamiento global referido a esta cuestión con tres claras líneas básicas modificar la metodología utilizada hasta ahora por el gobierno de rajoy

y plantear nuevas y concretas soluciones que nunca se le ocurrirán al gobierno de rajoy nuestro texto de enmienda que está recogido en gran medida

puntos de estas tres líneas básicas me gustaría destacar los más importantes

y a dicho efecto derogar la ley veintitrés barra dos mil trece reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema sustituyéndolo por nuevas fórmulas

claras fórmulas claras seguras y transparentes y menos regresivas restablecer como fórmula de actualización de las pensiones el de su vinculación al ipc

del fondo de reserva más allá del tres por ciento el real decreto ley veintiocho barra dos mil doce que les permite hacer lo que quieran sin

impulsar el incremento de los ingresos del sistema intensificando mecanismos de lucha contra la contratación irregular y el fraude de la cotización así como en su caso

del sistema mediante ingresos provenientes del sistema tributario gastos transparencia

y otras importantes medidas una herramienta una herramienta se hablaba del pacto de toledo todos los sistemas tienen este tipo de herramientas son necesarias

que el sistema debe tener en cada momento en el pacto de toledo improvisación absoluta hoy otro ejemplo con montoro no se lo toman en serio no se toman en serio esta herramienta solo hay que fijarse en la figura de su presidenta

cumplir la ley por lo menos cumplir las leyes orgánicas

iniciar las actuaciones conducentes a la inmediata transferencia a euskadi de la gestión del régimen económico hoy hemos avanzado hemos avanzado aquí

hemos superado el debate del cómo y del dónde con el tema que transamos yo creo que está superado

tienen otro problema no solo el cómo o el dónde tiene otro problema el cuándo el cuándo se les acaba el tiempo a ustedes

de esta no se van a poder escapar además de esta no se escapan

y solo hay una forma de enfrentarse digan la verdad lleguen a acuerdos y cumplan la ley eskerrik asko

diga la verdad sí sí y deje de hacer demagogia barata con todos los grupos de izquierdas de esta cámara en la que por supuesto les incluyo

lo que se hace cuando ustedes gobiernan y cuando están gobernando hoy porque ustedes gobiernan aquí no sé si se ha olvidado y ustedes gobiernan aquí

y estos señores han tenido sus gobiernos también por ahí bueno y aquellos señores tienen unos referentes fantásticos a la hora de saber qué hacen con las pensiones

iban los timadores vendiéndoles bibliotecas por sus casas hoy va el del gas

y me parece a mí me da la sensación de que todos ustedes están en esta misma

mire usted somos el único partido en españa hoy y en esta comunidad hoy que defiende el sistema público de pensiones que tenemos porque ninguno de ustedes se lo creen y si se lo creen mienten porque todos los discursos de los cuatro que han salido aquí

y nosotros somos el único partido que seguimos diciendo desde el principio que sí que nos encontramos el modelo quebrado claro que sí

porque este es un sistema de cotizantes solidario sí pero porque hay gente que cotiza hombre y a ver si dejan de hacer un poco

yo entiendo que a ustedes les hubiera gustado poder venir aquí a decir que es que el pp bajó las pensiones que es lo que hizo el psoe o lo que ha hecho podemos

señor hernández dos mil diecisiete

aplica el décimotercer recorte de pensiones en siete años estos son ustedes el cuarenta por ciento perdón el cuarenta en siete años el cuarenta por ciento pero esto era el año pasado este año siguen ten lo que hace la izquierda

de los mayores porque les importan un comino vienen aquí a hacer demagogia yo sí les voy a dar unos datos y digo que hacen demagogia

y han gobernado son el único partido que ha congelado las pensiones en este país el único con apoyos de otros unos se abstenían y otros votaban a favor y ahora se han bajado

que el señor maroto hace bufonadas oiga el señor sánchez votó

congelar las pensiones y propuso hace poco que vamos a inventarnos un impuesto a los bancos

ni el déficit del país vasco lo cubrimos con esa bufonada digan la verdad a la gente hay que decir la verdad pues digan la verdad de las cosas y de los números

desde el año dos mil siete la pensión media ha subido un cuarenta por ciento

que los pensionistas en españa son los que menor riesgo de pobreza tienen de toda la ocde

eso dice ese informe que la relación sueldo pensión es el más alta de la ocde el setenta por ciento eso dice ese informe eso dice ese informe

si es lo que es ya sé que les gustaría que fuera como ustedes

ya sé que les encantaría poder salir aquí a la tribuna a decir

roba a los señores mayores y a las señoras más pues lo siento mucho lo siento mucho e hicimos la reforma del dos mil trece para no bajarlas por qué

conforme a la inflación las pensiones verdad no les oía a ninguno de ustedes venir aquí a decir que había que referenciar la inflación

dónde estaban el año pasado hablando de esto demagogos baratos hombre señor pastor

nos dicen que qué hemos hecho nosotros oiga reformarlo para subirlas

y se reformó para que ningún gobierno pueda bajarlas o congelarlas como hizo el partido socialista con la inestimable ayuda del resto salvo el pp

y el cero coma veinticinco es el mínimo que sube porque aquí algunos se les ha llenado

que por cierto es un criterio europeo pero se les olvida a la hora de aplicar las medidas de sostenibilidad porque esa reforma del trece no dice que hay que subir el cero coma veinticinco dice que hay una horquilla mínimo sube el cero coma veinticinco

en función de la sostenibilidad del sistema cuando el sistema tenga superávit se podrá subir más del cero coma veinticinco pero con los gastos del sistema y los ingresos del sistema

es aquel que viene a decir que hay que subir ahora más a pesar de que no sea sostenible

lo siento mucho vamos a seguir trabajando para que no sea eso y no ocurra eso hombre

entre hombres y mujeres pues en fin el único gobierno que ha hecho algo ha sido el gobierno del partido popular claro señor quiere quitar todas las bonificaciones que tenemos claro tenemos

a usted le molestará nosotros consideramos que es una medida que corrige esa brecha salarial y la vamos a mantener y si podemos la incrementaremos

aunque a usted le parezca muy mal o cuando este gobierno de mariano rajoy consideró años cotizados los embarazos y los partos de mujeres de antes

congelar las pensiones sí yo me acuerdo que

para subir las pensiones de viudedad pero llegó el señor zapatero al gobierno y gobernó ocho años y se le olvidó y eso que no había crisis económica y es este gobierno el que lo

porque los sindicatos siguen mareando el decreto este gobierno el del partido popular el sistema vasco de pensiones yo es que de verdad no voy a perder mucho el tiempo

sin contar gastos de gestión que no sé por qué no hay que contarlos sin contar gastos tres mil millónes en un año el veinte por ciento de este presupuesto

y cuando nos hablan de competencias oiga todos ustedes han votado en contra de la propuesta nuestra que era transferencia sí conforme constitución estatuto y tribunal constitucional como lo tiene establecido

y yo creo que la prueba más palpable de que ninguno cree en el sistema es que todos dicen que hay que reformarlo pero ninguno nos dice qué

ni cómo y tiene que tener más ingresos eso sí a cuenta de los presupuesto del estado y de dónde salen los ingresos

le recordaré que tenemos un concierto económico que por cierto ayer celebramos el ciento cuarenta aniversario en el que esa es competencia nuestra y tendríamos que pagarlo nosotros el año pasado

de euros este año calcule usted

no se crea que con subir el veinte por ciento los impuestos recauda un veinte por ciento más no tiene que subirlo mucho más

cómo lo va a hacer y en cualquier caso les diré una cosa ustedes aquí están confundiendo lo que es un sistema de pensiones

y se cobra en función de lo que se ha cotizado y otra cosa muy distinta

y que cuando hablamos de dignidad rentas dignas

y da igual si las rentas son bajas porque vengan de pensiones de salarios del paro o porque no haya el que garantiza la dignidad del sistema

y en fin digo para los progresistas

cuando se planteó bajarlo el siete por ciento y lo siguen manteniendo eskerrik asko damborenea jauna

pero bueno nosotros hoy desde eh bildu seguimos defendiendo nuestra propuesta inicial nuestra moción inicial y eso no quita para que por compromiso con los

la enmienda transaccional la enmienda transaccional en la que también hay

que estaban en nuestra propuesta inicial incluso alguna modificación que luego trataré de explicar por qué digo que vamos a defender y seguimos defendiendo nuestra propuesta inicial porque hoy aquí también hemos visto como el partido popular que tenía hoy un papel complicado pero el señor damborenea sabe torear con eso y más

ha hecho una defensa de un sistema que según ellos son ellos los únicos que creen que es viable yo no he dicho

en inviable lo han convertido en inviable ustedes con sus gestiones y no solo con las modificaciones respecto a las leyes sobre las pensiones que han sido sangrantes sino lo que es aún más grave con lo que nutre al sistema de seguridad social

las cotizaciones de los y las trabajadoras y ustedes han dedicado a hacer que las cotizaciones de los y las trabajadoras cada vez sean más pequeñas

a hacer que el mercado laboral español sea lamentable con unos contratos de trabajo lamentables y con una situación

que esos trabajadores y trabajadoras que tienen que trabajar bajo esa legislación laboral que ustedes han hecho

liberal y de derechas que nos le preocupa absolutamente para nada el bienestar de los trabajadores

tienen un planto de comida caliente delante porque hay pensionistas en su casa que se lo llevan ese es el problema señores del partido popular

sin ningún tapujo por un sistema público de pensiones vasco porque lo he dicho aquí

y abogo por un estado vasco por lo tanto abogo por un sistema de pensiones vasco pero eso no quita

más adelante en otros plenos mi compañera nerea kortajarena sobre el bienestar de los pensionistas de hoy

y por eso creemos que es importante caminar hacia un sistema de pensiones vasco y por eso

meten el tema de la transferencia finalmente han admitido

y no solo la gestión económica porque como bien les he comentado en el estatuto de autonomía

del desarrollo legislativo y es fundamental también que transfiramos eso no hagámonos trampas al solitario

que tengamos eso porque para nosotros eso es un andamio para construir a posteriori un sistema vasco de pensiones eta azkenengo puntua

gehiengoak hala badio y esto es un principio democrático si la mayoría de este país en un momento dado es decir

decide que queremos caminar hacia un sistema público vasco de pensiones cuál es el problema es un principio democrático es una cuestión de derecho a decidir y eso es lo que ustedes no han querido poner en la enmienda transaccional

por su carácter democrático y lo digo por el representante del elkarrekin podemos no lo veía mal

no sé si es por el carácter democrático no democrático o por cualquier otro carácter pero les vengo a recordar que en el estatuto de autonomía mismo hay una frase bastante similar en la que se dice que admitir el estatuto de autonomía no significa que el pueblo vasco renuncie

tener pero claro parece que ahora en este no queremos hablar hablaremos en otros momentos de ellos pero es muy importante

a votar a favor de la enmienda transaccional sí eta bukatzera noa ia

porque creemos que hay que dar pasos y porque nosotros sí estamos comprometidos con los y las pensionistas como he dicho en mi primera intervención porque este tema nosotros lo hemos traído aquí en sucesivas ocasiones a lo largo de esta legislatura y en la legislatura pasada también lo trajimos

y los pensionistas de este país y con todas aquellas ciudadanas y ciudadanos de este país que nosotras desde eh bildu sí queremos que tengan una vida digna y lo tenemos claro

sí efectivamente como ha dicho la señora

yo no tengo en nuestro grupo no tenemos ningún problema que se recojan determinadas cuestiones

con debatir sobre el sistema propio de pensiones entre otras cosas porque

propio porque hay un sistema en estos momentos público que nos cubre y yo quiero

ese sistema que es público y quiero que se refuercen sus principios de solidaridad entre generaciones y también entre los diferentes territorios y naciones de nuestro estado esa es mi opción y por eso no tengo ningún problema en debatir sobre ello y por eso creo

nosotros estamos absolutamente convencidos y creemos en el sistema público de pensiones por mucho que el señor damborenea

incluso en ocasiones chulesco a decir que menos ellos todos los demás lo que queremos es cargarnos el sistema público de pensiones hombre no sé salgan ustedes y díganles a quienes se manifiestan en las calles que la culpa es de todos menos del partido popular

de manera deliberada el resto de partidos políticos de este país queremos cargarnos el sistema público de pensiones menos el partido popular eso no se lo cree ni los que les votan a ustedes fíjese lo que le digo ni los que les votan a ustedes se creen semejante barbaridad y además usted dice

que décimos que hay que reformar el sistema pero que no décimos ni cómo ni cuándo cuando lo que vamos a aprobar es una iniciativa una transacción con un montón de elementos del cómo con un montón de elementos del cómo

en cuanto se pueda por mí ya en cuanto el partido popular salga del gobierno de la moncloa por lo tanto

demagogia ha sido usted señor damborenea hasta tal punto que ha tenido que sacarme lo que hemos hecho nosotros en grecia

estuve de paso camino a chipre dos horas en el aeropuerto en atenas no vi nada de grecia más que el aeropuerto y usted recurre a semejante tontería

responsables de la crisis de los misiles o de alguna otra cuestión no sé la construcción del muro de berlín no sé si fue culpa mía directamente o no en fin

que salir aquí a defenderse y a vender

nosotros nos vamos a mantener desde luego en el discurso que he hecho que es un discurso ideológico sobre todo en la primera parte de mi intervención porque aunque a usted seguramente

nosotros creemos profundamente en esto hay un ataque deliberado al sistema público de pensiones y yo

porque se levantan una mañana dicen qué malos somos vamos a atacar al sistema público de pensiones

unos intereses económicos muy potentes que ven en las pensiones un nicho de mercado

un sistema de pensiones públicos sí raquítico que nos obligue a la gente a buscar complementos en pensiones privadas

de esa cuestión es de la que vienen las reformas que ustedes impulsan y pensamos que es importante comprenderlo y nosotros lo defendemos

podría referirme a algunas de las cuestiones que usted ha mencionado que no son ciertas nosotros no hemos hablado cuando hablamos de algunas de las bonificaciones a las que usted hace referencia nosotros hemos dicho y léase usted lo que hemos aprobado que no se sufraguen por este sistema que se sufraguen

sobre pensiones de viudedad etcétera sí eso no viene en la enmienda

no es lo que usted ha dicho en cualquier caso nosotros hemos presentado

con ellas pero lo que no puede usted es venir a decirnos que no proponemos cómo porque lo proponemos y usted no está de acuerdo y es muy legítimo que no esté de acuerdo pero no está de acuerdo porque detrás hay unos intereses económicos concretos y eso es lo que nosotros venimos a decir

gracias presidente mire señor damborenea con mucha tranquilidad

datos estadísticos no son invento del partido socialista entre dos mil cuatro y septiembre del dos mil once

la pensión mínima por jubilación a los sesenta y cinco años se incrementó en un cincuenta coma ocho por ciento

en ese periodo la inflación acumulada fue del veintidós coma ocho eso significa que las pensiones mínimas ganaron poder adquisitivo y superaron en veintiocho y trece puntos el índice de precios

para mayores de sesenta y cinco años datos estadísticos de un organismo que ahora controlan ustedes eso significa que el incremento fue de hasta tres veces superior al aumento de precio en esos años y el fondo de pensiones que ustedes dejaron con menos de veinte mil millónes lo dejamos

en casi setenta mil esos son los datos reales es verdad

de una parte de las pensiones porque las medias verdades suelen ser las peores mentiras

y las no contributivas subieron por encima del ipc solo se congelaron las pensiones altas esto es un detalle que a ustedes se les olvida permanentemente por cierto ese informe

sí dos mil siete ha dicho usted en esta tribuna bien en cualquier caso

supongo que ese informe a día de hoy no reflejaría una realidad tan magnífica para los pensionistas españoles y es verdad yo lo reconozco que el periodo anterior a zapatero en los mandatos de aznar se subió

una media de un tres coma siete de media cada año siete décimas más que el ipc pero en la época del psoe se subieron hasta casi un siete por ciento

que subieron un tres coma siete con aznar y entre un seis y un ocho y medio de promedio y son datos estadísticos no es la verdad inventada que ustedes cuentan y lo que es cierto

ustedes se ha fundido directamente la hucha de las pensiones hasta dejarlo por debajo

y el poder adquisitivo ha descendido un uno coma cuatro por ciento

pero eso no es mérito suyo es un problema de que los trabajadores han cotizado durante muchos años y les corresponde esa cotización así que

no les creen absolutamente nada y no tiene más que ver los miles y miles de personas que salen cada semana a protestar porque están angustiadas por la situación

que cuesta más el sello de la carta que les envió la señora bañez que lo que les han subido ustedes la pensión y eso es una realidad objetiva así que

que ahorren de dónde si malamente les llega para cubrir el fin de mes por eso nos importa lo más importante es que en este parlamento

hay una voluntad mayoritaria de mantener el sistema y de ligarlo al ipc es verdad que hubo tres años o cuatro en las que el ipc fue negativo pero ahí acabó la historia a partir de entonces eso no se ha dado eso no se ha dado

al ipc y esperemos que este debate nos sirva para reforzar el debate que se tendrá que producir y que se va a producir en el congreso de los diputados y por lo tanto allí ustedes se tendrán que retractar y recuperar lo que ha sido una dinámica hasta que ustedes llegaron

a la hora de abordar las reformas necesarias en las pensiones yo quiero agradecer a los grupos que hemos firmado la transacción pnv y nosotros y elkarrekin podemos el esfuerzo de responsabilidad que se ha hecho

a lo fundamental pero entienda usted que yo no puedo compartir la idea el sistema de pensiones fuera vasco estaría a salvo de inquietudes financieras y que si no lo fuera no la solución del sistema de pensiones es reforzar el sistema a nivel español y nosotros somos partidarios de la solidaridad intergeneracional e interterritorial y eso

no se hace ni más viable ni más factible ni más eficiente ni más sostenible esa es nuestra diferencia de fondo pero a pesar de todo lo he dicho al principio y lo digo ahora

amplia coincidencia y ahí quiero dejar el debate y espero que esto sirva de refuerzo al debate de verdad que se tenga que producir en el congreso de los diputados y que más pronto que tarde los pensionistas no tengan la necesidad de salir a la calle para defender lo que es suyo

eskerrik asko mahaiburu andrea berriro señor damborenea a mí me gusta escucharle

me lo tendré que hacer mirar seguramente me gusta escucharle normalmente hoy me ha gustado menos

demagogo y no por eso sino porque ha pasado

a no sé un poco al enfado y eso me da qué pensar y eso me da qué pensar sin más principios me los creo creo en ellos objetivos

como formación política nos planteamos desde la base de esos principios me los creo y creo que son conseguibles viabilidad del sistema me la creo y creo que es conseguible demagogia nos ha dado

hoy juego de manos yo no voy a decir lo que ha dicho el señor pastor juego de manos

ustedes son los que se encontraron con el modelo quebrado fotografía y ustedes son

los que se encontraron nos ha dicho aquí nosotros nos encontramos con el modelo quebrado fotografía nosotros constituimos el fondo de reserva fotografía

la segunda es cierta fotografía del modelo quebrado dos mil once

dos mil año dos mil señor damborenea no nos haga esos juegos de manos ustedes no se encuentran en el año dos mil con el sistema quebrado

ha mezclado las dos cuestiones ustedes se encuentran con el sistema de reparto

de esos ingresos de los ingresos vía cotizaciones ustedes se encuentran con el sistema de reparto con unas cotizaciones

en números redondos y unas prestaciones de ochenta y dos mil millónes

todos me pregunto todos y con anterioridad cuando no existía el fondo de reserva dónde iba ese diferencial dónde

hablando de ingresos cotizaciones que suben así prestaciones se cruzan en el dos mil once en el dos mil once el sistema como usted dice tampoco está quebrado se han cruzado se cruzan esas líneas

millónes de euros aproximadamente el sistema no está quebrado

y además tenía un resorte que es efectivamente el fondo de reserva para soportar esa cuestión

no utilice diferentes fotos de diferentes momentos eso es demagogia eso es demagogia

el tiempo señor damborenea y vuelvo al tiempo hoy aquí

hemos avanzado hoy aquí hemos avanzado diferentes posturas diferentes posturas que llegan a un mínimo común denominador

se mantiene en esa metodología sencillamente ocurre esto yo le diría y viendo lo que hoy se ha visto en esta cámara yo le diría sencillamente

digan la verdad digan la verdad lleguen a acuerdos

y cumplan la ley se lo he dicho en mi primera intervención el tiempo han utilizado el tiempo sistemáticamente y han utilizado el tiempo no

previsión del sistema no para generar propuestas que transformen el sistema en algo más

con ese objetivo el tiempo que ustedes han utilizado durante estos dieciséis años en parte desde el dos mil al dos mil diecisiete en parte porque es cierto que ha habido épocas

paréntesis en el que no estaban en el gobierno el tiempo que han utilizado ustedes lo han utilizado con un cálculo un cálculo

muchas gracias señora presidenta señor aiartza que se me ha olvidado en la primera intervención

cuando hablaba usted de demografía plan que por cierto seguimos esperando al de este gobierno que creo que tenemos un problema mayor que el del conjunto de españa pero bueno y dice hombre para mí es un debate serio dese usted cuenta que mi madre es viuda y pensionista para mí es muy serio yo quiero que mi madre como le he repetido más de una vez en esta tribuna siga cobrando su pensión

hay algunos señor hernández que ustedes prefieren que no haya cotizaciones sin son bajas sí

preferimos que no haya nada de eso y que haya cotizaciones sí sí pero de esas no había de esas no había oiga yo prefiero que haya alguien cotizando y devengando derechos aunque sea baja al principio desde ahora especialmente los jóvenes

entonces también me preocupan el sistema vasco yo

llevamos llevan cobrando su pensión desde hace ya once años el año pasado ya eran diez ya son once años gracias a la solidaridad nacional de la caja única de las pensiones porque somos deficitarios incluso antes de la crisis económica

desde el dos mil seis y aquí nadie me sigue y nadie me dice de dónde van a sacar el dinero tan fantástico el veinte por ciento del presupuesto de este año del gobierno

si el pp hubiera bajado las pensiones si hubiéramos hecho todo eso que usted decía

y le he sacado a syriza pero podría hablar porque le he dicho que me encanta que estén todos los de izquierdas juntos

en grecia el cuarenta por ciento de syriza va

es una broma el paraíso socialista que crean ustedes allí donde gobiernan pero se lo pongo a modo de ejemplo simplemente

me dicen sus propuestas concretas por favor su propuesta concreta el punto uno se lo he dicho

garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible si el papel lo aguanta todo pero sus propuestas ahora vamos a sus propuestas punto dos derogar la ley del dos mil trece esa que impidió que se bajaran las pensiones en el catorce en el quince y en el dieciséis a los pensionista porque les hubiera gustado a todos que les hubiéramos tenido que bajar porque estábamos referenciados al ipc pues mire usted no estamos de acuerdo

el único colectivo en españa que ha permanecido garantizando

en toda la crisis el único el único y siento que les moleste prohibir tercer punto la libre disposición del fondo de reservas les hubiera gustado que no hubiéramos echado mano del fondo de reserva que sí que lo creamos nosotros

que no se les pudiera pagar a los pensionistas lo sentimos mucho oiga lo vamos a seguir haciendo lo vamos a seguir haciendo

adoptar medidas para incrementar la financiación con cargo a los presupuestos del estado oiga con cargo a qué a qué partidas estas son sus propuestas señor hernández estas en concreto a qué partidas cinco usted me decía que he leído mal

así como de los gastos de gestión de las entidades

derogar la reforma laboral del doce claro que es la que impide que siga habiendo más parados y se empiece a crear empleo y cotizantes

y poco más pero señor pastor pensión de viudedad oiga que yo le hablo de la base que se tenía que haber subido la base

la base de la pensión de viudedad se le olvidó al señor zapatero en época de vacas gordas

cinco puntos tendría que haber subido la base hombre y del fondo de pensiones fundido rapiña del pp

que prácticamente desde que se crea el fondo ningún gobierno aporta al fondo todo lo que tenía que haber aportado ahora bien

ingresar un euro se lo fundió él sabe en qué

con la aportación de esos dos años el fondo hoy tenía que tener más de veinte mil millónes de euros

con los excedentes que había con los excedentes que había para pagar otras cosas a costa de los pensionistas

pero eso sí garantizando un sistema sostenible y justo eskerrik asko damborenea jauna

moción consecuencia de la interpelación sustanciada el día dieciséis de febrero referente al futuro del observatorio

presente se modifique lo antes posible efectivamente queremos hablar futuro del observatorio turístico de euskadi como una estructura potente que sea útil para el sector turístico que dé respuesta y que contribuya a las necesidades informativas de análisis y estudio de la actividad turística del comportamiento de los destinos

además de los datos internos y externos de otras fuentes y como herramienta última de futuro del departamento tenemos el plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte el eje siete

lo dedica a la estructura establecer un nuevo modelo de gestión y gobernanza y habla del modelo de gestión y qué modelo de gestión del sistema turístico

para que coordine el seguimiento de la estrategia turística vasca impulsar

para medir el rendimiento del sistema turístico del país vasco

territorial en la promoción turística vasca crear grupos de trabajo especializados en la gestión de aspectos específicos del sistema turístico y si vamos a las

y objetivos de implantación nos encontramos efectivamente con que el observatorio turístico vasco se activará

nos parece que este plazo es excesivo que tenemos mucho tiempo por delante de

y en la iniciativa veintiocho se dice que con el fin de tener información veraz sobre el rendimiento del sector y compartir esta información con el sector se impulsará el observatorio turístico vasco y esta

implantar el cuadro de mando para el seguimiento de la estrategia y adecuar el observatorio

a los requerimientos de un sistema de inteligencia competitiva del turismo y volvemos a utilizar dos nombres para el mismo o no observatorio turístico vasco observatorio de turismo de euskadi me decía el señor consejero en la interpelación que tengo tendencia a enredarse con los nombres me enredaré con los nombres y con muchas más cosas porque tengo un porcentaje de torpe

pero puede ser que también me influyan algunas lecturas obligadas como esta estrategia que me obliga a encontrarme con dos nombres distintos que desconozco

esa es la situación decíamos que consideramos el plan estratégico de turismo de comercio y consumo como una herramienta de futuro y esperamos que los vicios que arrastra del pasado

y que se amplíen las potencialidades que en el ámbito de la búsqueda de la creación y de la producción de datos para la gestión turística necesarios no me voy a extender más porque ya hablamos en la interpelación de todos los factores que son imprescindibles para la actividad turística y el plan estratégico enumera un montón de ejes y actividades lo importante yo creo es que hemos llegado a un acuerdo entre todos los grupos donde

los cinco puntos de la enmienda de transacción el parlamento vasco insta al gobierno vasco para que en el marco del plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte junto con los agentes del sector y la mesa de turismo defina e impulse la naturaleza y funciones de este observatorio turístico de euskadi a la mayor brevedad posible

que esto se puede adelantar se puede abreviar y que contemos efectivamente con ese observatorio que sea

en el segundo punto décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que traiga al parlamento antes de cuatro meses las conclusiones obtenidas para en esa mesa y en ese grupo de trabajo

sea conocido por los grupos de la cámara y podamos conocer de primera mano esas conclusiones el parlamento vasco décimos en el punto tres insta al gobierno vasco a que dote al observatorio turístico de euskadi de los medios técnicos humanos y necesarios

respuesta eficaz a los requerimientos de un sistema público de inteligencia competitiva del turismo señor consejero la interpelación puso de manifiesto que efectivamente

bueno nosotros creemos que el gobierno debe hacer un esfuerzo para que efectivamente ese observatorio cuente con los

para que pueda desarrollar su función de manera más eficaz para el sector en el punto cuatro décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que el observatorio

para poder determinar si el sector turístico vasco avanza hacia un modelo de mayor valor económico añadido

territorial y más sostenible desde la perspectiva de su impacto social y ambiental esto es muy importante lo vamos a tener que medir en todos los ámbitos y también me parece importante que en el sector de turismo se mida para ver cómo vamos progresando

y como quinto punto décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que mantenga como hasta el momento la actividad del observatorio

esas nuevas estructuras que se van a diseñar para este modelo de observatorio turístico de euskadi esa es la enmienda de transacción yo espero que

esto se cumpla lo antes posible que tengamos una referencia del sector turístico como se merece el propio sector

mucho tiempo a mejorar en la calidad del sector que ofrece en estar

técnicas más novedosas y por lo tanto nosotros como administración de apoyo tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tener una respuesta sólida a sus necesidades

buenos días a todas las parlamentarias hoy nos toca hablar sobre el observatorio turístico de euskadi y su futuro partiendo de una moción presentada por el grupo popular

realizó hace dos semanas al consejero de turismo comercio y consumo el señor retortillo si una escucha el debate que se produjo en el pleno de control

a buscar culpables que a encontrar soluciones un intercambio de reproches excusas y enredos

a los intereses electoralistas de los partidos implicados que a la toma de medidas concretas

la actividad del observatorio sin embargo hoy nos encontramos en un escenario completamente diferente todo indica

los partidos que sostienen el gobierno fundamentalmente han cambiado de parecer y están dispuestos a reconocer

plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte y existe un consenso entre todos los grupos parlamentarios

de reestructurar y definir las funciones de este órgano junto con los agentes del sector y la mesa de turismo nos parece un avance positivo y un pequeño paso pero un importante paso

para elkarrekin podemos es fundamental mejorar una herramienta que potencie la gestión inteligente de la información y el conocimiento

es ante todo un informe de la coyuntura del sector que nos ayuda a la toma de decisiones y al desarrollo de planteamientos y medidas futuras hoy en día el turismo está inmerso en un proceso de cambios y transformaciones y nos enfrentamos a nuevos retos y fenómenos

y repensar nuestras políticas para abordar con inteligencia

que este nuevo panorama plantea por ello

de nuestra sociedad es imprescindible tener una base para determinar los modelos de predicción

de nuestra comunidad a corto medio y largo plazo que se encargue de elaborar diagnósticos e informes

a los que se aplica en nuestro caso a euskadi

así como de controlar los resultados y la eficacia de las políticas turísticas y ayudar a su posible corrección un centro de investigación recopilación y procesamiento de datos e información de la actividad que sirva para proveer de manera constante a los diferentes agentes del sector turístico de informes y documentos útiles

y para la planificación de acciones sin olvidarnos del seguimiento y monitorización de las diferentes estrategias adecuándolas

de cada territorio para entender el turismo en euskadi tenemos que ser capaces de analizar estudiar y cuantificar los comportamientos de las turistas

económico cultural y ambiental que estos provocan según múltiples variables para avanzar entre todas hacia un modelo de turismo más sostenible y de calidad

una herramienta accesible actualizada y que sea útil al conjunto del sector turístico vasco para tomar decisiones a tiempo y con menor grado de incertidumbre y de riesgo que sea un referente y forme parte de un nuevo modelo de cultura corporativa más colaborativa a integradora que se coordine con otras comunidades autónomas

con el fin de mejorar la colaboración la comunicación y la rendición pública de cuentas y que ayude a las profesionales del turismo vasco a anticiparse y reaccionar ante los cambios del entorno alcanzando mayor éxito

e identificando las oportunidades y tal y como proponíamos en la enmienda que presentamos un observatorio que incluya los indicadores necesarios para poder determinar si el sector vasco avanza hacia un modelo de mayor económico añadido

y más sostenible desde la perspectiva de su impacto social y ambiental el observatorio turístico de euskadi fue creado en el año dos mil seis por el gobierno vasco

desarrollado en colaboración con el centro de investigación cooperativa cictourgune y está actualmente dividido en cuatro áreas diferentes

en torno a la necesidad de la activación de un nuevo modelo del observatorio turístico que apoye un crecimiento sostenible y resiliente del sector y que vigile y tenga en cuenta

por todo lo que hemos expuesto y agradeciendo la disposición del resto de grupos para establecer una base sólida de información tangible con miras a adoptar decisiones fundamentadas hemos firmado una enmienda de transacción que insta al gobierno vasco a incluir el observatorio en el nuevo modelo turístico el plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte en un plazo de cuatro meses y dotándolo de los medios técnicos y humanos necesarios para la gestión inteligente

pero desde elkarrekin podemos creemos que no nos podemos quedar aquí y tenemos que seguir avanzando para conseguir que las partes interesadas locales del sector turístico

en la medición de los riesgos costos impactos límites y oportunidades mediante un enfoque incluyente y participativo queremos hacer hincapié en el hecho

donde tenga lugar la reflexión y el debate sobre la realidad y el devenir de la actividad turística no queremos que simplemente se limite a ofrecer información útil y agregada a las empresas del sector ya que el observatorio turístico vasco

de investigación y de aprendizaje abierto que conlleve necesariamente reflexión y que cuente en todo momento con la colaboración de los principales destinatarios de los resultados una herramienta que se constituya como un foro abierto

establezcan sus necesidades de información y tengan la posibilidad de valorarla conjuntamente con vistas a tener
un instrumento realmente valioso para ellas mila esker eskerrik asko garcía andrea

esperamos que eso suponga un cierto punto de inflexión en la actitud que este departamento ha venido manteniendo hasta ahora porque es una actitud a la que para no sé podríamos calificarla

si hubiera sido una actitud ilustrada pero la verdad es que yo creo que este gobierno ha confundido liderazgo con autoritarismo y se ha creído autosuficiente para poder hacer y deshacer sin contar con los sectores en los que está interviniendo ni tampoco con los grupos de esta cámara pero decía que ya que tenemos un acuerdo no vamos a centrarnos en lo negativo sino que vamos a subrayar lo positivo y la esperanza de que esto sea un punto de inflexión para que no nos volvamos a encontrar con estas decisiones permanentemente unilaterales de las cuales el máximo exponente puede ser el plan estratégico

han sido las mínimas para cubrir el expediente y a los grupos se tramitará

precocinado al que no tendremos oportunidad de realizar ninguna aportación me resulta curioso también y creo que debo mencionarlo aunque no

que hayamos pedido desde euskal herria bildu que se introdujera también la consulta a los sindicatos a la hora de elaborar esta hoja de ruta para el nuevo observatorio turístico que necesitamos

que las dificultades iban a estar en convencer al partido popular mientras que el partido popular no tiene inconveniente

le molestan los sindicatos y una última reflexión nosotros creemos que la propia mesa de turismo tiene los instrumentos para poder albergar en su seno o con una relación muy directa ese observatorio de turismo que como vuelvo a repetir

a producir una serie de estadísticas o análisis numéricos sino que está también destinado a interpretarlas y a convertir en útiles todos esos datos y también a orientar la dirección en la que se recogen esos datos porque a veces ante los retos

determinados variables y nadie mejor que la propia mesa de turismo a través de la creación comisión de un grupo de trabajo que eso también está contemplado en su reglamento la que pueda llevar esa función de evaluación y de dirección de la orientación de la inteligencia económica en el sector del turismo pero eso ya sería una aportación hacer una fase posterior lo que sí tenemos con este acuerdo es una hoja de ruta sensata racional que

a una buena conclusión y a un buen observatorio turístico porque este sector económico tiene una enorme importancia tiene también

turístico contribuya a resolver solo me queda agradecer a los grupos

al grupo proponente que ha sido digamos el gestor de ese acuerdo eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta egun on consejeros señorías

de control del dieciséis de febrero en la que el consejero de turismo comercio y consumo ya explicó

que se creó en febrero de dos mil siete con el objetivo de generar conocimiento en torno al turismo

turístico en euskadi con una propuesta concreta ambiciosa rigurosa seria muy actual en ese momento y bien apegada al terreno aquella las áreas en que se organizaba aquella estructura

un área de estudios e investigaciones y un área de documentación y el plan de competitividad e innovación del turismo vasco dos mil diez dos mil trece recogía

en relación al plan por parte de basquetour el desarrollo de un observatorio turístico a modo de sistema de vigilancia competitiva un sistema accesible y de referencia para el sector que diese respuesta a las necesidades informativas de análisis y además de estudio de la actividad turística del comportamiento también de los destinos y de los mercados

implicados de los agentes del sector en dos mil doce se plantea una colaboración más directa con basquetour y se crea un puesto de trabajo en basquetour

el propio departamento a través de basquetour ese puesto de trabajo fue el de un experto en investigación social para hacer ese enlace entre las necesidades a plantear por basquetour y la investigación y el desarrollo tecnológico que realizaba

así las cosas lo que tenemos en dos mil quince es un observatorio turístico de euskadi que desarrolla en colaboración con basquetour que trabajaba esas cuatro áreas que les he comentado anteriormente al cerrarse en dos mil quince

entre otros se cierra también el observatorio turístico y queda

lo que es la carga automática de información de fuentes estadísticas

y no incluyéndose fuentes de datos que se incluían en su origen y el departamento tuvo entonces

en torno a una serie de indicadores eso sí mucho más limitada

respecto a esa herramienta con tecnalia en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y que tiene el nombre de observatorio turístico de euskadi

por tanto dos observatorios turísticos que son dos cosas distintas pero que tienen el mismo nombre

la diversidad de nombres que comentaba la señora lópez de ocariz el consejero y el departamento apuestan por mantener la inteligencia de mercado se mantienen las operaciones estadísticas ibiltur familitur y frontur y se pretenden incluir otros muchos estudios en nuevo observatorio

al área de turismo lo decía también el otro día la semana pasada los datos la información de flujos por ejemplo por la parte vieja de donostia san sebastián le interesan tanto al comercio como en este caso le interesaría a la gestión turística con el órgano estadístico específico y con el análisis que va a hacer entre otras cosas segittur entre otros entes segittur

se van a conocer primero cual es la información turística que está disponible

vasca qué se propone contratar cuáles serían sus costes y esto es lo que se pretende organizar

del departamento y que a la señora lópez de ocariz le parece pues muy extenso en el tiempo pero es que la cuestión es compleja esto no es una cuestión de yo determino y se hace hoy por artículo treinta y tres sino que quiere de unos procesos de unos procedimientos y de unos asesoramientos

tener un observatorio que desarrolle todas las potencialidades que en el ámbito de la búsqueda de la creación y de la producción de datos para la gestión turística se hace necesaria hoy en día

puesto que la estructura de un centro así ya lo comentó el consejero en

sobrepasa excede de las posibilidades de la administración vasca la persona técnica de investigación de basquetour es la que dirige

de los departamentos se implantara coherencia en los informes y en la documentación a elaborar en un marco de coordinación eso es lo que se pretende porque un observatorio es una estructura que diagnostica lo que se necesita después lo hace y lo integra con otros estudios e informaciones que tiene

respecto a la creación de un observatorio tecnalia ha mantenido una parte de la carga de datos

y abrió una página web el año pasado y como no se quiere prescindir de la inteligencia de mercado y como tampoco podemos conformarnos con lo que hay

por parte del departamento en lo que efectivamente puede llamarse un observatorio esa es la meta a conseguir por el departamento y por el gobierno vasco y lo digo para que no haya ninguna duda

la enmienda original que habíamos planteado los socialistas vascos junto al grupo nacionalistas vascos nos parecía más acertada y en consonancia con la iniciativa que había planteado en su origen

de la proponente y por eso instábamos al gobierno vasco para que en el marco del plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte concretamente

un modelo de monitorización y gestión del turismo

adecuada a las necesidades del departamento y coordinado por el órgano estadístico específico del departamento instábamos al gobierno a que dotase a dicho observatorio de los medios técnicos y humanos necesarios

público de inteligencia competitiva del turismo recuperando herramientas

específico del departamento y pretendíamos también que se estableciesen mecanismos ágiles y rápidos de intercambio de información con el sector entre los diferentes agentes y la administración

de una manera eficaz y eficiente y se nos presentó una propuesta de transacción ayer por la tarde noche a la que los socialistas hicimos una serie de apuntes y de correcciones que se nos han

tres de ellos no los cuatro que habíamos planteado a nosotros los socialistas creemos que con este acuerdo

tal y como resaltó el consejero por un sistema público de inteligencia competitiva del turismo

al observatorio turístico de euskadi de medios técnicos y humanos para que pueda dar una respuesta eficaz al mismo y estos son elementos importantes y destacables los que planteamos en esa propuesta de acuerdo o de consenso

socialistas vascos consideramos que son los más destacables en aras a obtener un acuerdo decía la señora garcía que parece que los partidos del gobierno

que sustentamos al gobierno y también los propios grupos políticos que forman parte de la oposición porque ellos también

hace una semana respecto al observatorio de comercio al señor casanova de euskal herria bildu decirle que el gobierno nunca ha pretendido

tenía muy claro que el ir hacia un nuevo modelo de observatorio era una necesidad de la propia gestión no se pretende y no se pretendía eliminar ningún instrumento

cuando se pueden hacer cambios en la gestión y adaptarla a los nuevos tiempos por tanto lo que el departamento quería era hacer y dar un sí a la mejora en la gestión a esa mejora en la creación de datos y a la hora de procesarlos decía usted que la actitud del gobierno en cuanto a liderazgo estaba contraponiéndose

más que liderazgo perdón se hablaba de autoritarismo para nada lo que se hace intervenir actuar contrastar debatir diagnosticar junto con el sector turístico en este caso para nada autoritarismo todo se debate todo se procesa y al final se acaba concluyendo con lo que las mayorías piensan por tanto sí al liderazgo desde luego para nada el autoritarismo

quizá lo que le pasa a usted es que peca de apriorismo

igual tiene usted un problema realmente con lo que aprobó la semana pasada respecto a los sindicatos y cómo hacer frente al hecho de que ellos están en contra de la externalización de servicios

sailburuak berak esan zuen que había que repensar todas las cuestiones de inteligencia de mercado de observatorios etcétera

en el decreto de estructura de este departamento que como dije en el anterior debate

que aglutina áreas que vienen de diferentes departamentos y que por tanto se tiene que reorganizar

nos dice que se pretende centrar la gestión en la promoción del turismo de la hostelería y del comercio incentivar sus sinergias y mejorar su interrelación

y para ello se plantea la coordinación de todos los ámbitos a nivel de los órganos superiores del departamento lo cual permitirá formular políticas transversales orientadas a las demandas de la sociedad

y el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles por tanto yo creo que hay aquí

una que es la transversalidad el trabajo conjunto de las diferentes áreas del departamento para poder aprovechar las

entre ellas y luego la del aprovechamiento la del óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles que creo que tampoco es baladí todo esto decía el señor

también la señora corcuera hacía hincapié en nuestra primera

además se anclaba muy bien en la primera propuesta que nos había hecho el partido popular la señora lópez de ocariz

haciendo referencia al plan estratégico de turismo comercio y consumo y anclando ahí en el eje siete en concreto en la iniciativa veintiocho las cuestiones que se planteaban en cualquier caso creo que es de felicitarnos que hayamos llegado a este acuerdo muy amplio como decía yo creo que acabamos esta serie o esta temporada de capítulos sobre esta cuestión

y yo agradezco a todos la disposición que ha habido y ánimo al departamento

a trabajar como estoy segura que lo harán en aras a cumplir este acuerdo eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea erantzunen txandara pasatuz

la buena disposición para llegar a este acuerdo y ahora nos queda seguir la actividad del departamento para ver si realmente se van aplicando

del propio departamento de la mesa de turismo nada más muchas gracias

una pena que no se encuentre aquí el objetivo de la iniciativa que traemos hoy

pide que el gobierno vasco destine fundamentalmente a gasto social el incremento de recaudación del año pasado pedimos que el excedente derivado de ese incremento una vez

mesedez isiltasuna una vez descontada la reducción de pasivos financieros se destine a políticas de empleo a educación y sanidad pública
a igualdad entre mujeres y hombres y en definitiva a gasto social

pero una responsabilidad bien entendida que no pone en riesgo

lo hace priorizando a las personas en ocasiones se ha explicado el dogma de la estabilidad presupuestaria a través de una metáfora o más bien a través de un mito el de ulises y las sirenas las sirenas embelesaban con su música a los marineros que saltaban del barco

y acababan muriendo ahogados en las aguas según el mito

al mismo tiempo que se ataba él mismo al mástil quería escuchar la música

sin correr su misma suerte hoy en euskadi en el ministerio de hacienda en bruselas algunos se creen ulises montoro

el señor azpiazu se creen ulises creen que las familias la ciudadanía son bellas sirenas a las que no hay que escuchar

el barco creen que su cometido su misión es ignorarles y en ello se empeñan en tapar los oídos de sus compañeros y sus compañeras en resistirse a sus justas demandas

la única enseñanza es que ulises por su propia decisión de atarse al mástil

cambiar la dirección del barco no puede tampoco comunicarse con sus propios marineros para que lo hagan por él el barco hoy en día va

no tiene rumbo porque algunos que se creen héroes han decidido dejar el barco el de todos y todas a merced del mar y del viento

la mano invisible que rige el bien común de este gobierno

quería pedirle al señor azpiazu que no sea ulises y le pido que sea prometeo que escoja revelarse

y que sea el protector de la ciudadanía vasca y hoy con esa propuesta tenemos una sencilla intención que es dar un sentido democrático y social a la finalidad del excedente de lo que la propia ciudadanía vasca ha pagado en impuestos la ciudadanía vasca

no quiere que se mantengan de forma encubierta los recortes en los servicios

la ciudadanía vasca quiere algo muy sencillo y es que los impuestos que paga que la riqueza que crea con su esfuerzo y con su trabajo se destine a mejorar su vida a mejorar la educación a mejorar la sanidad las políticas

y las políticas de igualdad y es que tal y como ustedes están aplicando la austeridad esta solo se traduce en priorizar el pago de la deuda

los recortes y en una austeridad mal entendida y sí sé que se han debatido en varias ocasiones

estas cuestiones en particular también hemos hablado del artículo ciento treinta y cinco ese famoso artículo de la constitución que con nocturnidad y alevosía

fue cambiado que después se concretó en otra ley sobre la que también hemos debatido largo y tendido que es la ley de estabilidad

la ley con la que el amigo del señor azpiazu el señor montoro ha atado de pies y manos a ayuntamientos e instituciones a muchas instituciones a esta al gobierno vasco curioso verdad o quizás no sea tan curioso a la vista de los pactos que tienen el partido nacionalista vasco y el partido popular

que se lleva saltando la ley de estabilidad presupuestaria año tras año sin que medie ningún

por parte del señor montoro que curioso y digo yo que será porque el partido popular les aprueban a ustedes los presupuestos y ustedes el pnv se los aprueban al señor mariano rajoy pues bien

puesto que se la salta puesto que no tiene ningún efecto saltársela para ustedes háganlo para dar una alegría a las familias vascas

para ayudarlas un poco en su día a día en que lleguen más desahogadas a fin de mes y eso es precisamente y

mismas familias han pagado en impuestos se invierta en mejorar su día a día en mejorar los servicios públicos que usan las políticas sociales que piden pero fíjense que no les estamos pidiendo ni tan siquiera que desatiendan la reducción de deuda ni tan siquiera les pedimos eso

que con esos millónes de euros que han pagado los vascos se mejore la educación pública

son muchas familias las que siguen atenazadas por la crisis y sé que esto nos lo han escuchado muchas veces pero le pediría al señor azpiazu que escuchase

a continuación pongamos encima de la mesa las necesidades de

para complementar sus sueldos de miseria en empleos basura pongamos encima de la mesa

esos que llevan meses en la calle reclamando pensiones dignas y sé que el señor azpiazu me diría que no puede decidir sobre las pensiones

a través de la renta de garantía de ingresos y asegurarles así un complemento digno a nuestros mayores pongamos en la mesa la situación de esas miles de familias que no disfrutan de este oasis vasco del gobierno de ese espejismo en el que este gobierno se ha instalado en la euskadi real

hogares un tercio del total de los hogares que no tienen ninguna persona activa en el oasis vasco tenemos

que queriendo trabajar no encuentran trabajo por qué no hacer que una parte de ese excedente

revierta directamente en estas familias y el señor azpiazu fue quien creó las expectativas no sé si recuerda hoy en día el señor azpiazu cuando vaticinó aquella lluvia de millónes del cupo o si recuerda con qué frivolidad vendió aquel pacto

pues nosotros le pedimos al señor azpiazu que cumpla que cumpla con su palabra

ha generado y que cumpla porque los presupuestos ramplones que se han aprobado para el año dos mil dieciocho

unos presupuestos que no trajeron precisamente una lluvia de millónes a la escuela pública y aún hoy pese a las bravuconadas de la señora uriarte está

dónde queda la apuesta de este gobierno por la educación pública y pregunto por la pública porque a la privada sí que le han llegado los millónes y de qué manera han llegado incluso

y es que hay otro colectivo también que no es precisamente pequeño que es más de la mitad de la población vasca son las mujeres que tampoco han visto ni rastro

no es prioridad acabar con la violencia machista ya lo dijo el lehendakari ahora ausente que no lo era y parece que fue un lapsus

sí se ponen todos los recursos necesarios para acabar con las violencias machistas déjense de declaraciones grandilocuentes de declaraciones institucionales y de fotos este ocho de marzo y demuestren su compromiso con hechos con presupuestos destinando el excedente de lo que pagaron las ciudadanas vascas hacer que vivan en plena libertad y es que frente a estas cuestiones que le he puesto

encima de la mesa este gobierno prefiere gastar el dinero

cuando malvenden a ecuador las que compraron hace no tantos años y no sé si el señor azpiazu

pero sí les reconozco que en hacer propaganda este gobierno se mueve como pez en el agua el excedente total de lakua rondará los seiscientos millónes

el ejecutivo de vitoria recibió setecientos veintinueve millónes más estimado en presupuestos el correo yo me pregunto dónde están esos millónes dónde se van a destinar los más de setecientos millónes de euros

a gastos que no son los que la ciudadanía quiere y demanda pues en elkarrekin podemos lo tenemos claro mientras el gobierno vasco sigue con sus lógicas

y neoliberales nosotros preferimos priorizar la inversión social hemos traído esta proposición no de ley hoy a debate a esta cámara

se destine a lo que es la ciudadanía demanda que se haga además descontado lo necesario para amortizar deuda que se destine a cuatro ejes prioritarios y de sentido común el primero que se refuercen las políticas de empleo es hora de ponerle el cascabel al gato es hora de dar respuesta

personas desempleadas registradas en lanbide a finales del año dos mil diecisiete ciento dieciséis mil personas que quieren trabajar

ni cómo el segundo la financiación de la educación pública una educación pública de calidad gratuita y para toda la ciudadanía miren nosotros no somos como el partido popular con el que pactan ustedes nosotros no les vamos a pedir

ni mucho menos nosotros no vamos a pedirles trece millónes de euros

como aceptaron el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi en los presupuestos del dos mil dieciocho

nosotros pedimos que el dinero público lo que pertenece a todos los vascos y vascas

el sistema educativo público vasco la educación de todos y de todas simple directo y claro en elkarrekin podemos no nos escondemos y esperamos que ustedes tampoco lo hagan esperamos que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi sobre todo el partido socialista de euskadi se moje de verdad por la escuela pública y tranquila señora corcuera que creo que va a salir usted que esta vez no vamos a ahondar como la vez anterior

a la escuela pública porque ya fue bastante bochornoso verles la semana pasada renunciar

tercer eje invertir en igualdad en una igualdad real

existe una grave contradicción entre las declaraciones del gobierno y los recursos reales que se destinan para la igualdad

el panorama ha sido todavía peor que en los presupuestos del dos mil diecisiete la inversión en políticas de igualdad y en contra de la violencia machista

y no hay trampa ni cartón una cifra totalmente insuficiente

de derechos que afecta directamente a la mitad de la población vasca y por eso pedimos que de esa lluvia de millónes del señor azpiazu llueva

último eje cuarto reforzar las políticas de inclusión social

reforzar los servicios sociales reforzar las políticas de vivienda en definitiva luchar por una sociedad más justa de verdad tienen ustedes en mente un mejor destino para el excedente de dos mil diecisiete que estos cuatro ejes de verdad puede haber algún partido en esta cámara que no esté de acuerdo con destinar el excedente de ingresos del ejercicio del dos mil diecisiete a estos cuatro ejes

que voten a favor de la enmienda que hemos transaccionado con euskal herria bildu que voten pensando en las personas

la escuela pública vasca la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusión social y acabo señores y señoras del pse les voy a recordar lo que dijo uno de sus barones

y leo literalmente tenemos a nuestro cargo los servicios públicos de nuestro país las costuras no aguantan más

a costa de descuadrar la vida de las personas por eso les pido que voten a favor de que usemos el excedente

y sean coherentes coherentes con la palabra dada la ciudadanía que les votó coherentes con sus principios y al menos demuestren que les quedan principios políticos y no lo hagan porque se lo pedimos desde elkarrekin podemos háganlo por la educación pública háganlo por las mujeres háganlo por el empleo y háganlo en definitiva

una manera de poner sobre la mesa una de las grandes injusticias

porque la realidad es que tenemos un superávit en el dos mil diecisiete otra cosa es por qué existe ese superávit

en el ejercicio de dos mil diecisiete hubiera sido unos ingresos

se podrían haber destinado por lo tanto alguien debería de haber negociado eso de otra manera pero detrás de esto hay muchas cuestiones el señor bollain ha puesto sobre la mesa el famoso y conocidísimo modificación del ciento treinta y cinco auspiciada por partido popular y partido socialista pero de aquello vino como bien él ha dicho la ley de estabilidad presupuestaria ley de estabilidad presupuestaria

se abstuvo y de aquella ley de estabilidad presupuestaria nos hemos encontrado a posteriori otras muchas cosas como

el techo de gasto que se tiene que aprobar en cada ejercicio

en julio y también el partido nacionalista vasco lo respaldó gauzak horrela

se presentó con mucha algarabía este superávit para el gobierno vasco y también el incremento de recaudación y bueno toda esta cuestión en el consejo vasco de fianzas

pocos días después diciendo que claro que había unas estrecheces marcadas e impuestas por el gobierno español que no dejaban que

que esas estrecheces marcadas por el gobierno español que como yo he dicho aquí muchas veces son marcadas por el gobierno español y no por europa

porque europa se las marca al gobierno español por su situación económica y por su no cumplimiento

como estado miembro al diputado de álava se le olvida que esas estrecheces han contado con la colaboración por un lado del partido socialista porque hizo actualmente socio de gobierno del señor ramírez porque

en la ley de estabilidad y refrendó el techo de gasto del ejercicio pasado por lo tanto a mí cuando

pues la verdad no sé si me entra la risa o la vergüenza ajena sinceramente

estos días cuando se nos dice como decía anteriormente el tema de las estrecheces que nos impone el estado haciendo un poco

he recordado que yo siempre le decía al anterior consejero de economía y al actual también y esta semana que estamos en la semana del ciento cuarenta aniversario del concierto económico creo que

el concierto económico también tiene cuestiones financieras pero se les olvida

o lo que es aún peor nos vienen aquí con supuestos acuerdos sobre límites de déficit límites de deuda y ya bueno el techo de gasto

porque lo pactan y lo votan en el congreso de los diputados con acuerdos que ustedes saben o deberían de saber que deberían de pactar

son meras casualidades los mismos límites que el señor montoro impone a las comunidades de régimen común

del aniversario del concierto económico creo que es oportuno también recordarles aquellos que dicen defender el concierto económico que también en el concierto económico están las cuestiones financieras y a ustedes se les olvida sistemáticamente o se les olvidan

o les viene bien olvidarlas quizás algunas veces les venga bien olvidarlas porque así ustedes mantienen ese halo

bollain de austeridad esas políticas auspiciadas por estamentos europeos

que al final lo que han hecho ha sido empobrecer a la ciudadanía europea a la ciudadanía vasca y limitar la posibilidad de liderazgo de los gobiernos porque hori dago ere mahai gainean gobernu honek

el señor consejero no está porque ya se ha gastado el dinero que usted le dicen que se tiene que gastar entonces el debate digamos que evidentemente le preocupa más bien poco entre otras cosas porque este debate llega pelín tarde porque desde octubre del año pasado de antes perdón desde el verano del año pasado ya sabíamos que íbamos a tener mayores ingresos y cuando en el mes de noviembre se presentaron los presupuestos para este año

el señor consejero nos explicó que era para adelantar básicamente gastos de este año aparte de la deuda que se llevaba más de la mitad o por amortización o por no emisión de deuda prevista más otros gastos sociales de inversión social que usted

su propuesta es muy genérica porque es que este gobierno todo es inversión social todo claro es que yo les oigo a los grupos que apoyan al gobierno

en este presupuesto no hay nada que no sea inversión social porque la inversión real hace ya tiempo

la creación de empleo vamos a ver

nos han hablado de la deuda de la regla de gasto de la ley de estabilidad cosa que en principio poco

a qué se dedican los mayores ingresos sobre los previstos que hemos tenido en ese ejercicio pero claro

esto de que nos inventamos determinadas reglas

financieras y que el déficit de más del tres por ciento creo que usted ha dicho que

bruselas no es que te toquen es que a ver yo

claro claro una serie de reglas y el déficit del tres por ciento se establecía ya allí y cuando algún país se pasa del tres por ciento

y si no tiene la opción de irse del euro irse del euro

no es que el pp o en este caso el psoe se haya inventado la ley de estabilidad no es que nosotros somos partidarios de estar en europa y en el euro hay países que no quieren estar en el euro pero otros que son muy afines a ustedes y decían tal no se han querido ir del euro

verdad es que es de libro entonces no nos hagamos trampas en el solitario nos han traído una propuesta

en fin tampoco sé qué tiene que ver el techo de gasto de los presupuestos del estado con los presupuestos del gobierno vasco o en qué gastamos o no los ingresos que tenemos aquí

en la que no se habla de nada de todo esto ni de la deuda

en la enmienda de bildu se decía lo contrario y han llegado ustedes a la transaccional en la que no se dice nada con lo cual pues uno ya se queda perplejo les felicito por su acuerdo no sabemos exactamente qué opinan

es que la iniciativa inicial decía que parte había que destinarlo a esa amortización de deuda

que de eso nada que lo primero la inversión social y la deuda lo último y el acuerdo al que han llegado es no hablamos de la deuda pero luego salen aquí los dos y se han pasado

hablándonos de la ley de estabilidad de la regla de gasto y al final

vuelvo a mi intervención inicial el señor consejero no está porque ya se ha gastado ese dinero excedente eskerrik asko

vamos a ver el consejo vasco de finanzas que se celebró el pasado trece de febrero adoptó diversos acuerdos entre ellos la liquidación de las aportaciones de las diputaciones forales

del fondo general de ajuste de dos mil diecisiete respecto a la liquidación de las aportaciones de las diputaciones hay varios aspectos a destacar

lo que supuso respecto al año dos mil dieciséis un incremento del once coma ocho por ciento

del concierto incorporó los acuerdos de ajuste del cupo y que han permitido computar también ingresos por ajustes

el incremento global de la recaudación si no se hubiese tenido en cuenta estas últimas cuestiones se hubiese situado en el cinco coma cinco por ciento partíamos

de las diputaciones forales que se incrementaban en un cero coma tres por ciento respecto al dos mil dieciséis y así se computaron como ingresos presupuestarios los incrementos de recaudación de dos mil diecisiete respecto a dos mil dieciséis por territorios son el trece por ciento en álava el once coma siete en bizkaia y el once coma tres en gipuzkoa un total de ciento seis millónes doscientos veintiséis mil cuatrocientos euros más respecto a la previsión de cierre

al final el importe final de la liquidación de las aportaciones de dos mil diecisiete ascendía a nueve mil ochocientos treinta y tres millónes y esto supone una liquidación positiva de setecientos veintinueve coma ocho millónes de euros más de los inicialmente o provisionalmente previstos que son

millónes de los desacuerdos o del planteamiento que hace aquí podemos y bildu la propuesta de podemos pretendía

inversión social ese excedente de recaudación una vez que se descontase la reducción de los pasivos financieros

utilizar prioritariamente ese incremento de recaudación en inversión social sobre el pago de la deuda y como decía el señor damborenea hete aquí que

que es obligado por normativa europea y de repente planteamos

y nosotros décimos que la propuesta de podemos los socialistas vascos décimos que la propuesta de podemos llega tarde a este debate seguramente para el proponente esto le importa bien poco porque él ya ha conseguido su cometido ustedes señoras y señores de podemos registraron esta iniciativa el dos de febrero

y para cuando ustedes plantean este asunto a debate han pasado ya tres plenos es decir vuelven a ir tarde y mal y encima presentan una enmienda

que se salta a la torera la legalidad vigente miren los socialistas establecimos en el acuerdo de gobierno en noviembre de dos mil dieciséis que íbamos a ser nos comprometíamos a tener y a hacer una gestión este era uno de los principios para un crecimiento económico responsable y transparente y decíamos que la gestión económica del gobierno vasco y del conjunto de instituciones vascas debía basarse en el principio del rigor y de la responsabilidad es preciso mantener señor bollain el saneamiento de las finanzas

pero además la sensibilidad y el compromiso con las necesidades básicas de las personas

de la acción de las instituciones públicas y en esos principios sigue estando

no le guste señor bollain usted pretende que no garanticemos los servicios públicos esenciales

sobre los que asentar la cohesión y la calidad de vida en euskadi usted debe estar en contra de que los socialistas estemos en esto y en definitiva

aliente en ninguno de los casos la desigualdad social y de ahí el compromiso de los socialistas vascos de abordar la consolidación de las cuentas públicas el rigor económico y presupuestario sin menoscabar nuestro nivel de bienestar los servicios públicos esenciales impulsando la economía productiva y el crecimiento

a consolidar un modelo de distribución de recursos que continúe garantizando la suficiencia financiera de las administraciones públicas vascas

y sobre estos principios adquiríamos los socialistas vascos el compromiso de mantener el objetivo del déficit público que corresponda a euskadi estabilizar

y recogidos en el plan de estabilidad del estado esta consolidación de las cuentas públicas se desarrollará sin afectar a las políticas sociales ni a los servicios públicos ese es nuestro compromiso el de los socialistas vascos junto con nacionalistas vascos en el acuerdo de gobierno

y ustedes nos plantean pues una enmienda ahora mismo ya de consenso con bildu que nos hace

a estos principios que ya están firmados y sellados señor bollain que yo creo que lo han hecho ustedes aposta porque menuda sorpresa si alguien

no se preocupe quédese tranquilo se propondrá a votación la enmienda a la que han llegado

esencial que le comentaba nosotros compartimos el destino los setecientos veintinueve millónes de euros extras que resultan del incremento de la recaudación de dos mil diecisiete

operaciones financieras la distribución era doscientos sesenta y seis millónes destinados a una menor emisión de deuda para cumplir la ley ciento treinta y ocho millónes al incremento del remanente que servirá para esa posible inversión social treinta millónes de euros más se destinaban a operaciones financieras como el instituto vasco de finanzas que también aprovecha para inversión social

se destinaban noventa y uno a compensar a los territorios históricos es decir diputaciones forales sabe para qué para los municipios vascos sabe por qué porque estos habían tenido retenciones hechas y no habían podido tener unos presupuestos digamos

más próximas a la ciudadanía los municipios son las instituciones más cercanas a la ciudadanía noventa y uno millónes para que

no tengan problemas a la hora de realizar sus programas de gobierno a la hora de atender las necesidades de la ciudadanía eso también son vascos también los que están en los municipios

social señor bollain cuarenta y cuatro millónes iban a servir para el adelanto de la cuarta parte de la paga dos mil doce a los funcionarios vascos

y ciento cincuenta millónes de euros se destinarían al gasto en materia educativa para becas para universidad inversiones en movilidad inversiones en salud

qué más con esta aplicación de los mayores recursos que se obtenía

promovemos por tanto una menor deuda y se hace inversión social señor bollain ya sé que no le gusta pero se hace inversión social

a los socialistas oiga practiquen la coherencia bueno pues mire desde que dijimos en campaña electoral y después de la campaña electoral los socialistas vascos dijimos idoia mendia nuestra secretaria general se comprometió a que nuestros escaños servirían para mejorar la vida de la ciudadanía vasca para poner como prioridad en la gestión del gobierno la agenda social

y en esos principios los socialistas vascos seguimos encontrándonos eso hicimos con el acuerdo de gobierno y en eso estamos apoyando y sustentando también a este gobierno otros mientras algunos nos comprometíamos dejábamos de estar en la pancarta otros como digo

hacían sus cálculos partidistas y decidían priorizar sus intereses como partido o como coalición

real en la gestión del gobierno siguieron estando en la pancarta y decidieron que serían otros los que tendrían que asumir ese reto bueno pues los socialistas vascos estamos en ese reto con un compromiso de a dónde van o a dónde han ido esos setecientos veintinueve millónes de euros

absolutamente irrealidad unas enmiendas consensuadas que no significan nada señor bollain absolutamente nada porque no pone ni la agenda social lo de hoy fue titular el dos de febrero en los medios de comunicación y punto y eso es lo que le interesa a usted que continuamente viene a debatir asuntos que ya han estado en prensa y bueno a ver si les damos un poquito a los socialistas

estamos satisfechos de cómo se están gestionando los dineros públicos

unos presupuestos los del dos mil diecisiete y los del dos mil dieciocho que ustedes sobre ustedes recaen la carga de la prueba nada más y muchas gracias

y lo que le tengo que decir es que precisamente eso es lo que el gobierno vasco está intentando no caer no caer en los cantos de sirena

atraer a los barcos de forma que pudieran encallar y el barco se quedaba hundido los marineros morían y los capitanes y todo

se olvida de las familias se olvida de las políticas sociales

errealitateak dioena esta es la verdad

usted solo ha pretendido traer aquí un debate con el ánimo de hacer el discurso demagógico que una y mil veces desde elkarrekin podemos están haciendo y eh bildu le ha entrado

es mentira porque ya no voy a decir que no es cierto que el gobierno vasco ha hecho negación de las políticas sociales ni las he hecho a lo largo de estos años según le he evidenciado con los datos

se va a destinar ese exceso de la recaudación porque acaso para usted los cinco millónes que han ido al departamento de salud para inversiones ni el hospital de eibar en el hospital

no es gasto social o acaso para usted los veinticinco millónes que van a inversión son inversiones efectivamente en alokabide para viviendas no son gasto social en vivienda públicas para alquiler no son gasto social

los más de cincuenta millónes que van al departamento de educación para financiar el contrato programa de las universidades para financiar

para financiar becas universitarias y no universitarias acaso para usted eso no es gasto social acaso para usted no es gasto social

para poder renovar las redes que están envejecidas porque algunas personas en algunos necesitan de redes actualizadas y necesitan de la mejora de esas inversiones para que la calidad de vida de las vascas y de los vascos mejore

que utilice el término despectivo locomotora para referirse a una inversión en movilidad en infraestructuras para mejorar la seguridad de las vascas y de los vascos también

para poder resistir la crisis en época de vacas flacas y en ningún caso responder a cantos de sirena y caer

y hambre para mañana que no es más que una política cortoplacista

decía la señora gorospe que es mentira que el gobierno vasco ha hecho dejación en sus funciones

hablar de políticas sociales y queremos hablar de inversión con criterios sociales y tomen nota a alguna alternativa la máquina que se usa en el hospital de basurto para hacer pruebas diagnósticas a enfermos de cáncer ha estado fuera de servicio varias semanas les propongo por ejemplo que invirtamos en una nueva

y que no esperemos a las limosnas de zara de inditex o de amancio ortega y eso podemos hacerlo

hablemos del colegio miribilla por citar uno hablemos del colegio público que tiene que cerrar aulas por goteras en el bilbao del guggenheim

socioeconómicos más bajos de euskadi hablemos también de las inversiones necesarias en otros centros como jakintza en donosti

tienen para elegir tienen para elegir el que mejor les parezca podemos seguir hablando de inversión con criterios sociales hablemos de lo que va a destinar en dos mil dieciocho este gobierno a las políticas de igualdad y contra las violencias machistas

se acuerda seguro señora gorospe de ese uno millón de euros

pues bien por qué no revertimos el recorte y destinamos como proponíamos nosotros veinticinco millónes de euros más a luchar contra las violencias machistas sería en vísperas del ocho de marzo un detalle que ustedes demostrasen su compromiso con la igualdad y con el cincuenta por ciento de la población vasca que va más allá de un parón de quince minutos o de iniciativas que no pasan de meros titulares y podemos hablar también de cómo invertir con criterios sociales ese excedente poniendo encima de la mesa por ejemplo

a empresas claves de nuestro tejido económico en nuestras comarcas más castigadas por la crisis industrial

como puede ser alfa en eibar o como puede ser tubos reunidos y le diría a la señora tapia pero seguro que el señor tellería se lo puede trasladar una tormenta en este motor fundamental de aiaraldea y una vez más la señora tapia llega tarde y mira para otro lado pero no solo es eso la señora san josé también

a inspección de trabajo por incumplimientos laborales en tubos reunidos por ejemplo

y tampoco queremos que se repitan situaciones como las que se han dado en múltiples empresas industriales en enkarterri que se les localizaron o cerraron por ejemplo

se acordará bien y casos como xey en zumaia que la señora tapia lo conoce bien y que pese a tener un paquete importante de acciones

y señoras y señores no queremos que vuelva a suceder lo mismo y por eso también hay que invertir ahí y hay que hacerlo con el mejor criterio posible

mantener nuestro tejido productivo y nuestra economía y eso también son alternativas sociales dónde van a destinarse estos más de setecientos millónes de euros porque las familias las personas

las personas que creemos en la educación y en la sanidad pública de verdad como motor de una sociedad que conviva en igualdad de oportunidades las mujeres que ven

por ciento del total del presupuesto a luchar por una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres se lo preguntan al señor azpiazu y se lo preguntan de verdad

cuarenta y cuatro millónes destinados a pagar el veinticinco por ciento de la paga extraordinaria pendiente de las personas funcionarias pero estamos locos o qué vamos estamos hablando

por cumplir cinco años después cinco años más tarde los derechos de trabajadores y trabajadoras de la administración vamos y esto no es un gasto para mejorar las políticas sociales es un derecho

a trabajadores y a trabajadoras durante cinco años porque son más de setecientos millónes de euros a repartir al antojo del señor azpiazu

pero es que de que este gobierno promueva un debate en este parlamento al respecto ni hablamos ni hablamos porque hemos tenido que ser nosotros y nosotras tarde pero hemos tenido que nosotros y nosotras quien lo ha traído aquí y ustedes

porque sinceramente me recuerda ese catorce de febrero con el pleno monográfico fiscal

alguna resolución pero esta vez estamos hablando

millónes de euros más de setecientos millónes de euros que este gobierno va a repartir a su antojo un dinero que supone un cuarenta por ciento

un dinero que supone el setenta por ciento del presupuesto del departamento de desarrollo económico y acabo

lo que pasa es que hace tiempo que ustedes no están ni detrás de la pancarta ni con la ciudadanía

hace demasiado tiempo que ustedes señores y señoras del partido socialista no están detrás de la pancarta y hablaba de sus escaños y del trigo sabes qué es lo que pasa que ustedes son la gasolina necesaria para el tractor que el señor rajoy le dejo al señor esteban y ahí necesarios pero sumisos

sigue siendo participe de los pactos entre la derecha eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

seguro llegará vamos a ver

yo sigo diciendo que por elkarrekin podemos ha llegado al debate tarde y mal señor bollain

es que ya se han tomado todas las decisiones como decía al comienzo de mi intervención y le he explicado

en qué se van a invertir esos setecientos veintinueve coma ocho millónes de euros

en plena descripción ciento noventa y cuatro se van a dedicar a la cuestión

social que es educación salud accesibilidad

a buen entendedor pocas palabras hacen falta señor bollain decía usted

ustedes no son coherentes mire si en dos mil diecisiete ustedes

no hubiesen apoyado el setenta y cinco por ciento de las propuestas que hacía el partido popular a los presupuestos del dos mil diecisiete oiga me viene usted aquí diciéndome que usted es coherente y yo pues chapó

es que les apoyaron el setenta y cinco por ciento a quién y al pp

que ahora dicen es que ustedes echaron gasolina cómo gasolina nosotros dígaselo a pablo iglesias y cuál fue su posición ante pedro sánchez

sea esto es el todo vale miren una recomendación

si ustedes hubieran participado en los presupuestos vascos desde el inicio comprometiéndose hoy estaría usted legitimado para decir por qué no se aplica

no vale venir aquí como el adalid de salvapresupuestos salvapatrias

en el inicio de esta legislatura así venía podemos dice fulanita que esta cosa está mal dice menganito que esto está mal como si ustedes estuvieran al pie de la calle y los demás debiéramos estar

en algún despacho sin salir de él pues mire no somos también ciudadanía

y pensamos en la calle y le digo más nuestro compromiso fue acordar acordar con los nacionalistas vascos

y eso es lo que hemos venido practicando porque la agenda social era necesaria que fuese prioritaria y no vale venir aquí con la pancarta de qué majo soy

no no no implíquese implíquese pacten los presupuestos diga que quiere estas cuestiones pacten los presupuestos con el gobierno y luego exija luego sí puede exigir

desde el hecho de decir como no me quieren no no que primero el dos mil diecisiete fue apoyando las enmiendas del partido popular y por va a quedar feo no me apunto al pacto

y no entraron a debatir los presupuestos es que ni siquiera quisieron debatirlos entonces no es serio y mire

es el día veintisiete de marzo y a mí sabe qué pasa que me parece que lo suyo es un postureo y está sobreactuando

debates ya caducos parece que usted

oiga hasta la saciedad del debate presupuestario hubo el debate para las enmiendas a la totalidad y el debate de las enmiendas parciales que no saliera usted en la totalidad no es culpa del partido socialista ni el grupo nacionalistas vascos eso se lo puedo asegurar entonces

en que le vuelvo a decir deje de practicar el sobreactuar porque el día internacional de teatro hasta el día veintisiete de marzo nos puede usted
en cierto modo hartar un poquito hala pues nada muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea

hubieran sido unos ingresos estándar a lo largo de los años correspondientes

se ha hecho el reparto al antojo del señor azpiazu ez da egin da gardentasun

a los medicamentos y productos sanitarios de uso vital para las enfermedades raras realizando revisiones periódicas y prosiguiendo con la mejora en el acceso a prestaciones

cartera común básica del sistema nacional de salud facilitando la derivación

por enfermedades raras y apoyando la creación de nuevos centros servicios

se hace necesario favorecer la investigación y continuar impulsando tanto medidas de diagnóstico precoz como la incorporación de nuevas detecciones de enfermedades al tiempo que se debe proseguir

y seguir dotando a los servicios de urgencia y los servicios de atención primaria de información sobre enfermedades raras

todo ello sobre la base de la implicación de las instituciones en el desarrollo del plan de actuación de enfermedades raras

de las peticiones en la directiva de movilidad sanitaria transfronteriza eusko legebiltzarrak beharrezkoa jotzen du gaixotasun arraroaren berezitasunak